biktimaren senideei eta aurrekoei el parlamento vasco condena la muerte violenta de erika tavares

o de discriminación sexual contra las mujeres entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave

derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres eusko legebiltzarrak herritarrei eskatzen die

que ayer tapia diga que se están poniendo encima de la mesa un montón de cuestiones y los grupos que sostienen al gobierno sean incapaces de traer una sola propuesta

azpiazuk argi utzi zion galdera parlamentario batzuetan que el gobierno no tiene pensado tomar medidas

pensado tomar medidas en este aspecto de qué hacer ante la escalada de la luz y decía más decía que el efecto va a ser pequeño yo le diría azpiazu que se le ha emborronado ha perdido

a menudo porque claro si se hacen esos diagnósticos después pues

ere hala izango da porque la realidad nos está pasando por encima y tenemos un problema gordísimo porque antes de la escalada de precios y antes de la covid esto ya afectaba a cerca de doscientos mil personas que cada vez son más las personas afectadas y no hacer nada

para nosotros no debe ser una opción baina errealismo printzipioari gaur ere zuen gehiengo osoa gailenduko zaio

bereziki badagoela bat hay una que es especialmente

de los beneficios ilegítimos los beneficios extraordinarios que vienen siendo producidos por el alza extraordinaria del precio del gas que como dije la otra vez el precio del gas o subida puede explicar que el precio que la luz general a través del gas sea cara pero

es que toda la electricidad sea cara esto está generando unos beneficios multimillónarios multimillónarios de miles de millónes de euros y en cuanto se ha puesto encima de la mesa la medida para recortar esos beneficios multimillónarios

una guerra se ha abierto una guerra desde las eléctricas con la amenaza de cierre de nucleares

en energías renovables con la compra de políticos

si con la manipulación de las diferentes fuentes de generación para aumentar artificialmente los precios gerra batean gaude eta kontsumitzaileak eta industria

de ariete a las empresas lo que

todos los arietes que tiene disponibles para doblegar la voluntad del gobierno de retocar esos beneficios ilegítimos

es que uno de los principales arietes en estos momentos de cara a la estrategia de las grandes eléctricas es el pnv es el pnv

pero la estrategia del pnv en toda esta historia está siendo completamente alineada y completamente acompasada para favorecer los intereses de las grandes eléctricas a mi modo de ver a nuestro modo de ver no tiene sentido

cuando las renovables podían haber tenido seguridad jurídica si hubieran estado a la

que había ofrecido el gobierno no tiene sentido que ayer aitor esteban hable de medida simplona los recortes

cuando ahora mismo es el mecanismo más efectivo y el que más incidencia va a tener en la reducción de la tarifa de la electricidad y para mí de entre la ensalada de propuestas que salieron yo he leído el comunicado no escuché las declaraciones de arantxa tapia

es que se pase todos los cargos se pasen

y esto es para mí especialmente perverso primero porque la minoración de los cargos era precisamente

se van a recoger por parte del estado y se van a dedicar a pagar los cargos que es de dónde lógicamente tendría que venir este dinero sin embargo

una cosa muy diferente que es que el estado se haga directamente cargo de esos cargos para que baje la factura de la electricidad dijo de las empresas yo entiendo que quería decir de todos y dijo cuarenta cuarenta y cinco por ciento cuando creo
que quería decir veinte por ciento porque es un veinte por ciento los cargos el otro veinte por ciento son los peajes y desde luego ahí no entraríamos pero luego podemos discutir luego amaitu mesedez bai amaitzen dut segituan

es decir que todos terminaríamos pagando una subvención

y mantendríamos intactos los beneficios ilegítimos que están

esa es la jugada lo que pasa que es un poco difícil de explicar para cuando lo sabe porque las cuestiones de la eléctrica sí que son complicadas ea zer diozuen eta gero jarraitzen dugun

nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad porque no compartimos la que ha presentado eh bildu no contempla realmente

concretas para bajar el precio real de la factura eléctrica

a explicar ustedes en el primer punto de su moción hablan de que los productores de electricidad reciban solo remuneraciones justas el problema es

esa afirmación qué es justo quién decide si lo es o no lo es esta afirmación es inaceptable puesto que abre la puerta a la fijación de precios por tecnología sin atender al coste real de las compañías productoras

ustedes hablan del perfil del consumidor del autoconsumo el consumidor vulnerable

autoconsumo son dos tipos de perfiles distintos y esta medida de ningún modo favorece a los consumidores que no pueden pagar la factura y le voy a decir más

siempre habla eh bildu para independizarse de las productoras de la red pero que lo único que se ha independizado es de la realidad en el punto número tres ustedes hablan de hacer

ya en nuestra propuesta llevamos incrementar las ayudas a los consumidores vulnerables y eso puede hacerse rápido y pueda estar listo antes de la llegada del invierno en su moción los puntos cuatro

van en esta dirección luego podemos hablar de lo que de los cien millónes de euros de la

promovida por el partido nacionalista que no entendemos por qué no lo ha hecho ya puesto que vuelvo a decir ustedes fueron

pública una comercializadora pública es una empresa que compra energía al precio de mercado y que la vende a los consumidores a un precio que les reporta margen de beneficio las comercializadoras no modifican el precio del mercado

si lo que insinúa es que una comercializadora tiene que vender a pérdidas esto presenta un problema con la competencia y puede ser

una actividad ilegal con respecto a las ayudas sociales los ciudadanos vascos tenemos

el bono social térmico las ayudas de emergencia y la lucha contra la pobreza que es una ayuda que entrega

al bono social térmico a fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno los usuarios o los destinatarios siguen sin cobrar la prestación de dos mil veinte que por otro lado es una ayuda nacional pero bueno si realmente es para usuarios vulnerables pues todavía no lo han cobrado esta situación

reflexionar sobre la eficacia de las ayudas si llegan con un retraso de un año

ya que la cuantía media del bono térmico es de setenta y cuatro euros por todo un año y es verdad que

dichas ayudas para llegar a muy pocos y la cuantía de verdad que es insuficiente

respondió la consejera de igualdad justicia y políticas sociales en dos mil veintiuno

en un doce por ciento cuando el coste de la electricidad se ha doblado y el número de beneficiarios se ha multiplicado tenemos que hacer

ningún vasco se quede sin poder encender la calefacción por falta de recursos

las ayudas para paliar la pobreza energética llegan a muy pocos según una encuesta de familias y hogares vascos elaborada por el departamento de igualdad justicia y políticas sociales del gobierno vasco en dos mil diecinueve ciento sesenta y uno mil quinientos setenta y seis personas declararon tener recursos insuficientes

y gas o las bombonas de butano en dos mil veinte las ayudas llegaron de entre cincuenta y uno mil y sesenta y ocho mil ochocientos personas estas ayudas de emergencia son complementarias creemos que si ampliamos la potencia hasta los quince kilovatios para el consumidor doméstico podemos conseguir

es una medida concreta que se puede implementar y que ayudaría a muchas familias

llegaríamos a familias numerosas y a jóvenes que comparten piso porque estos son los usuarios que ven aumentada la potencia contratada la iniciativa que

no pide modificar el real decreto ley por el que a partir del uno de enero de dos mil veintidós el iva subirá del diez por ciento al veintiuno por ciento nosotros pedimos modificar la ley treinta y uno barra

sea permanente y poder converger con el resto de países europeos en nuestra iniciativa instamos al gobierno de españa a simplificar la factura para facilitar su comprensión instamos al gobierno de españa a suprimir el iva de la producción de energía eléctrica

eléctrico instamos a que el gobierno de españa modifique la ley veinticuatro barra dos mil trece del sector eléctrico para que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica sean financiados íntegramente a cargo de los presupuestos del estado instamos a desvincular la tarifa regulada de la volatilidad del mercado al por mayor de la electricidad tal y como se está aplicando

europeos señores les animo de verdad a votar a favor de nuestra enmienda porque realmente es la única que ofrece una rebaja del coste de la factura

bueno egun on estamos ante un debate que

para la vida de la ciudadanía y también

de este país y estamos básicamente ante dos posiciones

como decía el señor otero y es que aquí hay una parte una serie de grupos parlamentarios que han hecho una defensa enconada y en los últimos tiempos además cada vez con mayor virulencia en defensa de un oligopolio energético que está chantajeando y amenazando a un gobierno

y luego una serie de grupos parlamentarios que consideran que este chantaje y estas amenazas en relación con las medidas que quiere aplicar el gobierno de coalición suponen una afrenta para los consumidores las consumidoras y

cínicamente planteando que lo que hace falta hacer es una rebaja de la factura a través y a cargo de los presupuestos para así

muy cínico porque esa rebaja de la factura

al consumidor el consumidor también la acabará pagando a través de las arcas desde luego a través de la fórmula que el partido popular y el partido nacionalista vasco han planteado quien desde luego sí que no pierde es el oligopolio energético

la factura o en su caso a través de las arcas

mediante la retirada impositiva o en su caso derivando

la situación de la factura y del alza del coste en los presupuestos la realidad es que

una situación que es estructural un sistema de subasta

el agua a precio de whisky y la realidad es que esta situación en algún momento tendrá que tendrá que adaptarse estamos

del precio del gas en relación con el resto también de las energías

generación de energía propia en nuestro país lo cual ahonda más el problema y en crisis

estas debilidades estructurales pero desde luego

lo que tiene que darse es una corresponsabilidad entre las empresas energéticas y la administración pública lo que no se puede es eliminar de la ecuación la responsabilidad del oligopolio energético y creemos además

en ellas para disponer de mayor capacidad operativa a la hora de actuar con respecto al mercado energético y una de las propuestas que a nuestro entender en la transacción es más es más relevante es la necesidad de abordar un planteamiento de constitución de una empresa pública de energía o en su caso como figura también en la transacción

del eve que este actúe también además de como generador de energía propia como comercializadora y en la medida en que genere propia y a su vez comercialice con la misma podremos no depender tanto de un oligopolio energético que veremos si efectivamente no desvirtúa incluso las lógicas

si no están ya bastante desviadas

también en relación con ciertas declaraciones que se han hecho los últimos días por parte de miembros del partido nacionalista vasco o incluso por la señora tapia

van a resolver el problema que en estos momentos está encima de la mesa creemos que amenazar incluso

que el decreto si no es adaptado bajo las premisas del interés del oligopolio incluso el gobierno

puede caer nos parece de una irresponsabilidad

en estas declaraciones también está la razón de ser de que ahora mismo no tengamos un texto

y el pnv en la medida en que difícilmente

entiendo los miembros del partido socialista aceptar las premisas que el pnv está marcando en estos momentos a nivel estatal tanto en el congreso de los diputados como públicamente en relación con el decreto que hoy mismo se va a debatir en el congreso de los diputados y en este sentido sí que invitaríamos a que el partido socialista en su caso que estamos convencidos

hubiese previsiblemente transaccionado y acordado un texto común con en este caso eh bildu nosotros y nosotras decir que y en este sentido quiero ir a ciertas de las medidas que planteó la señora tapia creemos que

que la solución pasa por una reducción impositiva y por que las cargas sean asumidas en los presupuestos generales del estado y básicamente esa es la fórmula que plantean exactamente la misma que el pp y que

pues pueden apoyar la iniciativa del grupo parlamentario pp y ciudadanos también comentó la señora tapia ayer que instaba a fomentar

un mercado a plazo pero nos tememos que será una tarifa plana que siempre

bilaterales en estos momentos seguramente que el oligopolio cuando lo considere renegociará dicha tarifa plana para su propio beneficio y en este sentido

en el problema del alza de la factura por otro lado además también instaba en su petición a la comisión europea que se favorezca el uso de recursos propios del gas natural no sabemos si y además esto ha sido

si volvemos nuevamente a poner encima de la mesa el gas de

la cuestión de la soberanía energética a la necesidad de explorar gas

y luego por otro lado si leyesemos entre líneas no solo con respecto a las declaraciones de ayer sino con lo que ha venido sucediendo

del gobierno vasco respecto a las energéticas decir que para nosotros

a determinadas a determinado conglomerado compuesto por repsol petronor grupo mondragon iberdrola bahía de bizkaia y nortegas de hecho cuando se habla de eficiencia energética de los edificios

es que utilicemos los fondos europeos para la rehabilitación en beneficio de la fundación opengela formada por gobierno vasco y repsol a su vez también cuando se habla de generar energías renovables de todo tipo a nuestro entender lo que se quiere decir es que se

de ekiola formada por el grupo mondragon y gobierno vasco y en la que participa indirectamente también repsol mediante la empresa ekiluz y también creemos que cuando se

o se plantea tramitar las conexiones eléctricas y gasistas transeuropeas creemos que se vuelven a favorecer a empresas gasísticas como nortegas y bahía

del oligopolio para que sigan con el negocio del gas

en nuestro país y creemos que este no es el modelo

esto que vienen siendo las políticas de los últimos años del gobierno vasco

y de llevar a término la iniciativa público privada en lo que respecta a este tipo de inversiones luego redunda en que cuando toca defender a las energéticas porque el gobierno en este caso de coalición quiere sacar un decreto

sus beneficios extraordinarios e ilegítimos

negocios que ha venido gestando a lo largo de los últimos tiempos pues tiene que salir en defensa obviamente del oligopolio sin ya

en la réplica si surge en lo que respecta a las puertas giratorias que entendemos también que opera y de buena manera en la articulación

de la posición del partido nacionalista vasco

interesante apasionante pero muy complejo tema a debate hoy aquí en esta cámara hace ya un tiempo me advertía un buen amigo economista me decía si te han explicado

y lo has entendido es que te lo han explicado mal entonces advirtiendo de la complejidad de este tema y advirtiendo también que el que les habla no es un experto en la materia

no solo en las causas sino en algunas de las consecuencias evidentes y no tan evidentes

esta escalada del precio de la electricidad para terminar haciendo una reflexión sobre qué se ha hecho y qué se debería de hacer bueno al hablar de las causas algunas ya son más que evidentes en la interpelación

que se pasó aquí la semana pasada tuvimos

como la señora consejera sobre las diferentes cuestiones por ejemplo el tema del gas del que siempre

de la geopolítica en la que es tan difícil o casi imposible poder actuar de forma rápida y efectiva

es el precio de los derechos de las emisiones de ce o dos yo creo que es momento también de reflexionar sobre

burbuja especulativa cuando algo una herramienta que servía para intentar encauzar y dirigir la transición ecológica se ha convertido en

simplemente a la mera especulación sin otro interés que el enriquecimiento inmediato y rápido y la rentabilidad

yo creo que requiere cierta reflexión si ese mercado a nivel europeo está funcionando o tenemos que darle una pensada y para finalizar dentro de las causas la que yo creo que de alguna forma está teniendo mayor actualidad que es la compleja estructura del cálculo del coste de la energía

que encima tiene como advertía ya hace tiempo la catedrática de economía natalia fabra tiene esa especie de virtualidad

porque las variaciones que ocurran en la producción de la energía más cara que sin embargo representa un diez por ciento del total de la producción energética esa variación al aplicarse al resto de todas las producciones pues genera un efecto multiplicador y a pequeñas variaciones que haya en el gas

a la totalidad y multiplicadas ampliando yo creo que esta es una cuestión desde luego que nos tiene que hacer pensar

y desde luego dónde está posiblemente la actuación más rápida inmediata para poder encauzar esta situación pasando al capítulo de consecuencias algunas son obvias se han hablado hoy aquí se lleva hablando en la prensa

desde agosto septiembre en todos los lados la cuestión del riesgo de aumentar la pobreza energética la exclusión social

últimamente mucho el riesgo que corremos de comprometer la competitividad de nuestras empresas también habría que hablar de las maniobras de chantaje

cautivas a las empresas más consumidores de energía y que desde luego no podemos aceptar pero también me gustaría hablar de una consecuencia que quizá ha pasado más velada

lo advertía la ministra teresa ribera los consumidores no entienden la razón por la que los esfuerzos en el despliegue de energías renovables no se traducen de manera más directa e inmediatamente en facturas de luz más baratas posiblemente estas cuestiones estos debates

que difícilmente va a apostar por la electrificación de la economía viendo la que les está cayendo constantemente encima

su defensa de la actuación del gobierno de españa yo creo que es un hito histórico también en la historia del parlamentarismo vasco como ve nuestros

parecidos y yo creo que podríamos de alguna forma estar bastante de acuerdo es verdad que usted es muy tiquismiquis y posiblemente haya matices

que es un diagnóstico bastante compartido lo que no comparto es el hecho de que no se está haciendo nada yo creo que desde el primer minuto y usted lo sabe señor otero

ha liderado una serie de medidas muy importantes muy importantes y se ha puesto en primera línea tomando

pequeño repaso de las diferentes medidas que se han venido tomando en los últimos meses

energético que va a permitir reducir progresivamente la factura de la luz al retirar de los costes del sistema eléctrico

de minoración de ce o dos a las centrales no emisoras tres en la misma dirección y hoy muy de actualidad porque se está debatiendo en el congreso de los diputados el diseño de un mecanismo

cuatro prórroga de la suspensión del impuesto sobre la venta de producción de energía eléctrica que como ustedes bien saben

cinco reducción del impuesto especial sobre la electricidad que pasa del cinco coma uno a cero coma cinco que como también saben ustedes es el tipo mínimo permitido por la normativa europea

ampliación en novecientos millónes del límite del importe recaudado con las subastas europeas de ce o dos para cubrir costes del sistema eléctrico siete subastas de tecnologías

ocho aprobación del suministro mínimo vital que protege a los consumidores más vulnerables las compañías eléctricas no podrán interrumpir el suministro en caso de impago

nueve modificación de la ley de aguas para regularizar el agua embalsada reconociéndola como bien de primer orden social y ambiental diez celebración de la primera subasta renovable once convocatoria de próximas subastas el próximo día diecinueve de octubre se celebrará

doce se han destinado más de trescientos millónes de euros a la financiación de proyectos renovables innovadores y trece

al diez por ciento hasta el treinta y uno de diciembre lo cual tendrá un impacto directo en veintisiete millónes de hogares autónomos y empresas

les tengo que decir a todos ustedes que queda mucho por hacer queda mucho por hacer y los socialistas estamos absolutamente convencidos que este reto que no solamente es coyuntural sino estructural necesita de más europa de más europa

es por ello que desde el primer momento también la ministra teresa rivera se puso a la cabeza

con una noticia un poco tibia y esperemos que los resultados electorales

nos permita ser más ambiciosos también en lo social en el contexto europeo

realizadas por el gobierno de españa podríamos resumirlas en dos fundamentales una la necesidad

europea que centralice la compra de gas natural así como que facilite la creación de reservas estratégicas y dos

para que los combustibles fósiles no sean los que marquen el precio y poder así trasladar

es mucho lo que está en juego en este debate insisto algunas de estas medidas son anteriores o del uno de junio anteriores a esta gran tormenta de los precios de la electricidad

un paso estructural que tenemos que dar y que no podemos dejar en absoluto aparcado en un muelle a la espera de mejores tiempos es el momento de que todos y todas arrimemos el hombro pero

nadie por muy legítimo que sea su interés nadie puede pretender chantajear a la ciudadanía y tampoco a sus representantes que somos nosotros

la resistencia al cambio es una reacción legítima sin embargo el intentar frenar una transición necesaria no es más que una torpeza que difícilmente podrá comprender la sociedad

egun on guztiei decía un filósofo alemán de cuyo nombre

de la revolución conservadora en el reino unido que si en el dominio de lo estético

en el dominio de lo ético el debate fundamental es

el debate fundamental es entre amigo y enemigo y curiosamente a pesar de lo carca de aquel filósofo alemán de cuyo nombre sigo sin querer acordarme ese esa en la clave en la que funciona

de esta cámara estos son mis enemigos y además todos mis enemigos son amigos entre ellos

y yo he presentado aquí una moción y se siente herido el señor otero

ya le vamos conociendo vimos cómo fue la interpelación porque las formas en política también importan usted viene interpela a la consejera la consejera le contesta y usted hace toda su intervención no en base a lo que la consejera le ha contestado sino a lo que no le ha dicho y luego hoy nos trae una moción

ha derivado en un debate en el que el problema se ha superado el gobierno de españa lo hace todo bien ustedes les apoyan ellos obviamente se apoyan a sí mismos y nosotros veremos cómo se

que también les apoyemos insisten ustedes en esa visión amigo enemigo las derechas las izquierdas

en el desarrollo de ese real decreto ley en cualquier caso

mañana mismo la consejera como ustedes han adelantado también

opinión creemos que no es el momento aquí y en esta cámara porque digo el gobierno de españa lo hace maravilloso miel sobre hojuelas todo para delante y resulta que el gobierno que no tiene capacidad para incidir directamente en los precios de la luz

perdón el pnv porque en su visión de amigo enemigo mi enemigo

y entonces nosotros no hemos presentado una enmienda a su propuesta primero porque creemos que no hay que alimentar la confrontación entre los agentes implicados en el precio de la luz que es lo que hacen ustedes

en este tema sino intentar ser agentes activos en la solución

se obvia continuamente que estamos ante un problema mundial que afecta al conjunto del problema no solo eso todavía hay quien se toma la libertad de atacar a la consejera por replicar exactamente

la unión europea decía ayer mismo hoy aquí

en otras instituciones en las últimas semanas hemos visto que también no se crean

veníamos a otra cosa y asimismo en el desarrollo de la moción

opinión se intuye cierto desconocimiento sobre la complejidad de la fórmula del coste de la energía como decía el señor alonso es complicada es complicada pero si para defender nuestras posiciones tenemos que pasar a la demagogia política o

este gobierno aquel gobierno las compañías o cualquier actor de los que ya hemos situado en el plano de enemigos pues lo tenemos complicado porque aquí

insisto más allá de propuestas generalistas sin definir nos encontramos en una coyuntura internacional de precios energéticos altos y que

y qué es luego lo que sube el precio

diecinueve en la que el precio de los derechos de emisión todavía

para estabilizarse no en algo yo creo que sí compartimos todos y es que

de forma inmediata habrá que ver cómo dónde

porque estamos hablando de mantenimiento de puestos de trabajo del futuro de la economía de mayor recaudación de impuestos y de políticas sociales

pero que hay que tener también en cuenta todas las consecuencias que tienen estas decisiones este último decreto ley

además creemos que está hecho con la mejor voluntad del mundo y no solo respecto del consumidor doméstico sino también de cara

si las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales estamos ante un problema estamos ante un problema además

con visos a futuro no hace falta decirlo es verdad qué ha pasado estos días con las compensaciones que han recibido por cuestiones parecidas de hace diez años a nosotros lo que nos preocupa es que algunas empresas estén ya parando su producción y que esto nos aboque a nuevos

por lo tanto décimos que estando de acuerdo con la base de ese real decreto ley hay que aclarar las cosas y hay que impedir que aquellas empresas que tienen fuentes de energía diversificadas

y no es aceptable no es aceptable que las eléctricas utilicen a las empresas como ariete para sus propios intereses pero también es verdad

primero y en esto creo que estaremos de acuerdo aunque he oído cosas que me han extrañado un poco estaremos de acuerdo que no se puede modificar el sistema marginalista que se utiliza para fijar los precios de la electricidad porque su modificación

me atrevería y si no me equivoco ayer he leído que china va a asumir algo parecido por lo tanto se puede intentar presionar a europa para que estudie alguna posible modificación porque los costes tanto variables como fijos de las distintas tecnologías hoy difieren mucho unos de otros

y si no podemos modificar el sistema marginalista que está en manos de europa y tampoco los peajes porque están en manos de la comisión nacional del mercado de la competencia

adoptar medidas que incidan o bien en los impuestos o bien en los

cargos y eso es lo que decía ayer europa amaitu mesedez bai bukatzera noa iba a bueno suficiente eskerrik asko

señor grajales que me ha enseñado que en política

cómo era que había un filósofo no sé si era alemán que decía que en política la ecuación primera que había que resolver

enemigo aquí estamos los amigos enemigos y se ve que todo el mundo está entrando en esa ecuación política pero además es curioso porque la foto tiene un montón de simbolismo

porque esto es lo último que pasó antes que galán dijera que lo que está pasando es que hay un intervencionismo terrorífico por parte del gobierno del estado es decir lo terrible lo terrorífico no es la situación en la que se están quedando

no lo terrorífico es que el gobierno le meta mano

es interesante porque esto no es una continuación de los argumentos o no es una repetición de los argumentos anteriores

en el congreso las intervenciones de los partidos acerca de la aprobación o no de la validación del decreto con las medidas

la abstención y anuncia la abstención porque por mucho que ustedes insistan en que

hay una por la que ustedes no están dispuestos a pasar y es la minoración de los beneficios extraordinarios entre los costes de generación y los costes de venta

y esa es su dependencia con las grandes eléctricas y específicamente y ese es el eje de toda su estrategia en esta historia horregatik gaur ez duzue ezer aurkeztu horregatik guk egin ditugun proposamen inguruan

no sé si es el subconsciente o el consciente o dónde están pero usted lo ha vuelto a repetir

aitor esteban ayer y es uno de los principales motivos para que hoy se estén absteniendo en madrid

que las pérdidas y lo acaba de decir que las pérdidas de las empresas eléctricas las están repercutiendo sobre los consumidores industriales y yo le digo mentira no son pérdidas son beneficios ilegítimos y le contesto a muriel larrea hablando de lo que es justo y lo que no es justo cobrar

hoy se han negociado y se han vendido cuatrocientos treinta y nueve mil megavatios a una media de doscientos quince el megavatio esos son noventa y cuatro millónes de euros hace justo un año esto se negoció no a doscientos quince euros sino a treinta y ocho euros el megavatio y cobraron los productores dieciséis millónes de euros hoy noventa y cuatro millónes de euros hay setenta y siete millónes de euros de diferencia una parte

entre ciclo combinado y cogeneración no llega al veinticinco por ciento eso quiere decir que el setenta y cinco por ciento restante que se está generando al mismo precio que el año pasado o muy parecido

hoy alrededor de sesenta millónes de euros hoy hoy a este ritmo vamos a unos beneficios caídos del cielo que van a rondar

y el gobierno ha dicho que le va a meter mano y nosotros décimos que sí que está bien pero que hay que apretar que había margen hasta los siete mil millónes de euros

aun con la metida de mano se van a llevar varios miles de millónes de euros de beneficios extraordinarios

ayer no son pérdidas no son pérdidas y no son esas supuestas pérdidas

no es primero el sistema de fijación de precios marginalista que permite

sobre esto a usted no le oigo decir nada al pp tampoco coinciden casualmente el psoe con la ministra calviño con varios ministros de europa ha echado ese intento para que se retribuya justamente que es lo que decíamos en nuestro primer punto y que no entiendo por qué el pse por ejemplo a ese primer punto no se suma hoy porque

decía el señor grajales que la solución no está en esta casa

pero lo que sí está en esta casa es ayudar a los ciudadanos vulnerables

esto sí que está en esta casa por eso nuestra enmienda va

los kilovatios a los que se puedan acoger las personas que son vulnerables y miren les voy a decir una cosa también al señor grajales fíjese es que me ha hecho mucha gracia

los errores en política los pagamos todos los ciudadanos por lo tanto la buena voluntad

las voluntades no solucionan muchas veces las cosas y con respecto a lo que dice el señor otero mire según el boletín mensual de la red eléctrica en agosto de dos mil veintiuno la demanda fue la demanda de energía fue un cero coma siete por ciento inferior respecto

la producción de renovables creció un siete coma uno por ciento mientras que la de no renovables disminuyó un trece coma ocho por ciento por lo tanto

y con un peso mayor de las renovables con respecto al precio de las emisiones de ce o dos el último

frente al incremento del uno coma nueve del dos mil veinte o sea del de respecto al dos mil diecinueve

más recauda el gobierno con este concepto por lo tanto

es el responsable del aumento del veinte por ciento del precio de la electricidad

también comparto que podemos afirmar que el gas y el precio de ce o dos incrementan la factura el coste de la energía

de la electricidad pero lo que no comparto con ustedes es que el mercado mayorista no debe de funcionar a través de subastas horarias o del sistema marginalista porque como usted ha dicho realmente el año pasado costaba unos treinta y ocho euros el megavatio

mirando ustedes también hablan de los beneficios del margen de beneficio mire

las centrales ustedes decía en la intervención en la interpelación decía que

y estaba vendiendo a más de doscientos verdad en aquel momento pues le diré que las centrales hidroeléctricas son un negocio cuando están funcionando

que depende en gran medida de la existencia de reservas de agua y el ejemplo es ricobayo que lleva nueve meses con la instalación parada por lo tanto lleva nueve meses sin producir con esto qué quiero decirle señor otero que tenemos las medidas que ustedes están apoyando en el gobierno

están pagando más por su factura que la solución está en su tejado que podían utilizar

y podían destinarlo a rebajar la factura de los ciudadanos y lo que necesitan los ciudadanos es una

no pueden vivir más estamos creando estamos generando y estamos viviendo muchos más ciudadanos en euskadi que sufren pobreza energética que este invierno no van a encender la calefacción porque no van a poder calentar sus casas porque no van a

vamos a poner medidas eficientes inmediatas para los ciudadanos gracias eskerrik asko larrea

a mí me sorprende esa manera de echar la pelota hacia

no opera no podemos opinar respecto a si el sistema marginal es adecuado o no es adecuado si es justo o no es justo porque respecto a eso no he escuchado al pnv pronunciarse

y es absolutamente legítimo que el oligopolio energético saque partido de este sistema concreto pero al pnv no le he escuchado al pnv lo que sí que le he escuchado es que se va a abstener es que se va a abstener

hoy y a razón de una cuestión muy clara y además que aquí ya se ha puesto encima de la mesa que es la intervención término que utiliza también el pnv

el único quid del real decreto que no comparte el partido nacionalista vasco es decir que en lo que respecta a la cuestión de fondo lo que el pnv

del alza de los precios en estos momentos que quien asuma la responsabilidad íntegra en estos momentos del alza de los precios sea la administración

la última parte de la intervención del portavoz del partido socialista que ha dicho precisamente que ir en dirección contraria

y a lo que la ciudadanía pide traerá consigo lo que traerá consigo y planteaba además en el primer punto y se ha dicho

modificar el sistema marginal y así lo ha trasladado en europa ese es el quid de la cuestión y es donde existe una falla en lo que respecta al acuerdo

de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno y vuelvo a decir que para nosotros la fórmula en ningún caso

de la factura en la rebaja impositiva y además es que resulta sorprendente que lo diga el partido popular cuando parte de los impuestos y de las cargas que figuran en la factura las implantó el partido popular en su momento

que determinados elementos impositivos de la factura hay que eliminarlos cuando en su momento fueron ustedes

absoluto nos parece de un cinismo absoluto y en estos casos sí el estado tiene que hacerse cargo del oligopolio como en su caso con la banca financiera y el sistema financiero la crisis del dos mil ocho en esos casos sí que opera lo público pero cuando respecta

lo público no opera porque es pérdida en fin

nosotros desde luego no les entendemos respecto a su posicionamiento ideológico y efectivamente que es un problema estructural

del estado ni aquí podemos atacar podemos resolver en eso estamos de acuerdo

de manera sustancial con respecto a lo que ahora mismo estamos viviendo pero medidas se han puesto encima de la mesa el

enumerado algunas de ellas y la que hoy se tramita en el congreso de los diputados es fundamental y algunas de las que hoy figuran en la transacción entre eh bildu

fundamental creemos que es fundamental todo lo que respecta a activar además lo que impulsó también el partido nacionalista vasco

de cara al ámbito municipal en el sistema de sostenibilidad energética en la ley de sostenibilidad energética que se aprobó la legislatura anterior y los fondos que deben de ser activados y a día de hoy no se han activado del mismo modo que consideramos

de energía pública que transcienda el eve o que en su caso a través del eve este actúe además de como generador

pública que es algo que ya se está dando en otras comunidades autónomas que ya se ha puesto en marcha en otras comunidades

hacerlo también en euskadi y nuestro grupo parlamentario en el congreso también lo ha planteado para que así sea

soluciones y propuestas sí se ponen encima de la mesa en el campo en el que podemos actuar

lo único que dice es que aquí el que tiene que responder al alza de los precios de la factura

también por parte de quien ahora mismo lo único que está haciendo es chantajear amenazar y en su caso

de nucleares o incluso repercutir el coste del alza o de la pérdida de beneficios que como bien se ha dicho no lo son porque son absolutamente ilegítimos

en su caso consideren en estos momentos en estos momentos como enemigo al oligopolio eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

andrea yo creo que con esta segunda ronda ha quedado más claro si cabe

enemigos y los enemigos son todos amigos

del debate yo señor soto a mí no se me ocurre decirle de qué puede hablar de qué no puede hablar usted en este pleno estaría bueno usted puede decir lo que quiera también le digo que por favor no diga el pnv no ha dicho lo que sí le voy a pedir es que me escuche cuando hablo eso sí le voy a pedir y que usted puede opinar lo que quiera usted puede opinar lo que le dé la gana yo también puedo opinar muchas cosas pero sabe qué problema tengo yo

no yo pero que mi grupo apoya a un gobierno y hay muchas cosas que no podemos decir porque gobernamos para todos y gobernamos desde una legalidad ah pues mire qué le voy a decir me da usted una envidia tremenda la que tiene usted de participar en un gobierno

y ancha es castilla lo que haga el gobierno o lo que deje de hacer en cualquier caso bien todo correcto

obviamente el debate importante estaba en madrid y tampoco veía muy claro el que aquí le hiciesemos una réplica pero

hubo un panel de expertos en los cuales estaban representados todos muchos partidos y yo creo que dieron las claves para reducir la factura y este supergobierno yo creo que

o por no decir ninguna de las medidas que ahí se proponían

digo lo mismo que antes yo creo que en la buena dirección

nacional a mí realmente

me preocupa me preocupan estos debates me preocupa que oh por el oligopolio oh por el pnv las puertas giratorias bueno pues bien si esa es su manera de hacer política

que hay que introducir otro tipo de señales en los hogares en las empresas

esas medidas coyunturales que se están tomando y que se van a tomar hoy se deben transformar e ir mucho más allá desarrollar un nuevo mercado generación distribuida redes de interconexión entre consumidores

y ese es el debate que hoy debía darse en madrid y que de alguna manera hemos trasladado aquí tenemos que seguir hacia unos objetivos que hoy son necesarios

en un proceso de transición ecológica sostenible pero las controversias que hemos apuntado nos hacen concluir además que las reformas

sobre la competitividad la equidad la cohesión territorial y la social la transición

tiene un problema que deberemos asumir entre todos entre la sociedad entre los sectores económicos e industriales

pérdidas de renta para aquellos colectivos más vulnerables y para sectores cuyo proceso de descarbonización sea mucho más complejo más lento

y acompañarles también a realizar esas nuevas inversiones porque si no lo hacemos desde luego difícilmente vamos a poder involucrar a la sociedad en todo este proceso también tenemos una oportunidad en ese sentido con los fondos

nosotros señora consejera a lo nuestro mañana

y desde luego como siempre le digo cuente con nosotros para llevar adelante aquellas en las que sí podemos incidir aquí que quizá ese debía ser debía haber sido el debate de hoy y no el decir si alguien está el oligopolio si alguien es un agente al servicio

se dedica a llevarse el cepillo la iglesia de san pedro todos los domingos porque todas las acusaciones

ese creo que es el debate y a pesar de este debate y a pesar de su actitud nosotros en lo que podamos hacer en lo que podamos poner por delante

egun on legebiltzarkideok no puedo empezar a hablar de infancia sin tener un recuerdo para los dos niños que antes de ayer eran testigos y víctimas directas de un feminicidio más en esta ciudad asistían al asesinato de su madre

violencia que es ejercida contra las mujeres pero también

en una sociedad en la que el machismo sigue encontrando fórmulas para su expresión esperamos que las palabras y compromisos que

la consejera sobre el apoyo a ambos menores sean efectivas y desde todos los ámbitos institucionales y sociales sepamos acompañar a esos dos menores y a su entorno en la recuperación y reparación por la violencia que han sufrido

pretende ser nuestro aporte a la lucha contra la pobreza infantil que no deja de ser otra forma de expresión de la violencia contra la infancia con el derecho a ser niño o niña con el respeto escrupuloso a sus derechos humanos y a no ver condicionado el desarrollo personal y comunitario de ningún niño o niña por carencias que son estructurales y de entre todos ellos cabe destacar las desventajas específicas que enfrentan niños y niñas y adolescentes en situaciones familiares precarias

los que tienen problemas de salud mental niños y niñas migrantes o en situación de tránsito o los que requieren cuidados alternativos o sufren privación severa en materia de vivienda decía en la interpelación lo recuerdo hoy que la última encuesta de pobreza y desigualdad social de dos mil veinte realizada el pasado verano

ha aumentado un punto y medio en dos años la tasa más alta desde dos mil ocho y esto es solo el principio de lo que van a ser las consecuencias de esta crisis

porque algunos son muy duros y hay que interpretarlos con voluntad política de cambio esta moción que traemos hoy aquí responde

para ese cambio porque el aumento de la desigualdad aunque solo sea experimentada por un diez por ciento de la población significa que hay vecinos y vecinas nuestras que a diario tienen que escoger entre comer o pagar el alquiler y que hay niños y niñas que se ven profundamente afectadas por la vulnerabilidad y precariedad del hogar en el que viven

niños y niñas en su mayoría afectados por la segregación escolar por las tasas de concentración del sistema educativo con aquellos cuyas familias

con quienes viven en familias que tienen que elegir entre comprar ropa o poner la calefacción y lo más grave es que hay niños y niñas en euskadi que han reconocido haber pasado hambre

este año todavía tenemos un muro de contención que está funcionando resistiendo más o menos bien pero la brecha de la desigualdad se agranda las crisis

y todas las alertas están poniendo el aviso sobre el impacto

y quiero destacar aquí el valor del escudo social desplegado desde el ministerio de derechos sociales que ha venido a ampliar el marco de las políticas públicas y el enfoque de derechos de la infancia aquí también en euskadi desde elkarrekin podemos e izquierda unida estamos dispuestas a trabajar y a hacer todos los esfuerzos necesarios por aportar y trabajar

por eso hoy vamos a llegar a un acuerdo aun a sabiendas de que nos queda una sensación agridulce respecto al consenso alcanzado agridulce porque consideramos que todas tenéis ya la enmienda transaccional podéis seguir punto a punto

del menor en todas las políticas públicas es un importante avance y que la futura ley de derechos de la infancia deberá recoger todas las medidas necesarias para que se cumpla pero también

y aún no se ha hecho en segundo lugar porque valoramos de forma positiva el desarrollo de un programa de garantía infantil para euskadi que además sume esfuerzos al plan nacional que ayer mismo se avanzaba

y que reconoce la trascendencia de que la gobernanza multinivel funcione para que todos los niños y niñas vean sus derechos fundamentales protegidos y promovidos también que se incluya el valor estratégico del fondo social europeo plus que permite

en tercer lugar porque entendemos positiva la prórroga de aukerak suspertzen para dos mil veintidós y avanzar en la mejora de la situación socioeconómica de las familias con menores a cargo

al apoyo al alumnado de familias vulnerables y con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje y el acceso gratuito de la infancia y la adolescencia

esto supone un avance en el bienestar integral de nuestros niños y niñas y en su inclusión social sobre todo aquellos y aquellas que no que no han sido tenido en cuenta cuando la pandemia

mientras el programa de garantía infantil se esté diseñando es imprescindible que el proyecto de presupuestos de este año incluya entre sus objetivos la lucha contra la pobreza infantil y como una política transversal y coordinada desde varios departamentos

estamos de acuerdo en que la reforma del sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social debe mejorar la protección de las familias más vulnerables y específicamente en las que hay menores

para incorporar un consenso común sobre demandas muy concretas que poníamos en nuestra propuesta original como era la de establecer un índice de referencia claro o asegurar la formación especializada de todo el personal de lanbide en la aplicación del interés superior del menor digo

podamos incorporar sin embargo hay un punto que no hemos podido alcanzar de acuerdo y un aspecto que para nosotras era fundamental

y sinceramente el gobierno vasco aquí tendrá que explicar por qué desaprovecha esta oportunidad de unos fondos que suponen una mejora

y no solo es una valoración de nuestro grupo sino que el propio texto de la recomendación de la unión europea sobre garantía infantil así lo indica

nosotras seguiremos insistiendo y estaremos atentas a la coordinación y al encaje del programa de garantía infantil de euskadi

no puede pasar desapercibida hay que plantear

y eso solo se hace con el incremento de las rentas familiares y del sistema de protección social con mejora de la equidad en la educación con mejora de la atención sanitaria con mejora de la atención a la salud bucodental y a la salud mental de niños y niñas con blindaje de los derechos básicos de la infancia

que son necesarias para vivir techo digno alimentación digna y entorno digno tampoco nos vamos a olvidar de estas demandas como tampoco vamos a dejar caer en el olvido la propuesta de la creación y diseño de una prestación específica contra la pobreza infantil para familias

ahora no la ven pero no vamos a dejar de trabajar por que llegue a ser una realidad en nuestra comunidad por eso aun con esta sensación

suscribimos desde mi grupo parlamentario junto con nacionalistas y socialistas vascos este acuerdo con la vista puesta en que a veces

y seguir presionando que al final es la labor de la oposición es necesario encontrarse en puntos intermedios

de inmovilidad es necesario también acordarse de que detrás de las cifras hay niños y niñas que sufren que se han visto despojados del derecho a su infancia

que es necesario dejar de acostumbrarnos a la pobreza infantil y como les decía en la interpelación

transmisión intergeneracional de la pobreza porque no podemos condenar a un niño o a una niña a la pobreza durante toda su vida simplemente por haber nacido en determinada familia y que es tan injusto como arbitrario

a que voten a favor de nuestra enmienda transaccional eskerrik asko eskerrik asko

gustado que se hubiera introducido algunos de los puntos que nosotros contemplamos en nuestra enmienda a la totalidad como así se lo he dicho a la proponente

consejera en la interpelación y en su contestación a la misma cuando hizo referencia

programas transversales en áreas como la economía el empleo la educación la salud la inclusión social la violencia de género

con los niños y niñas que puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad y nos parecía

que realizó la consejera y lo entendimos como un compromiso y así lo hemos recogido en el primer punto sí que lamentamos que no se haya al final recogido en la enmienda de transacción pero bueno como consideramos que otros de los puntos a los que hacíamos referencia en nuestra enmienda a la totalidad sí se han recogido pues finalmente

a apoyar nos parecía importante como decía anteriormente el dar cumplimiento al acuerdo parlamentario de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho

y actuaciones de las administraciones públicas esto es algo que está pendiente es un acuerdo de hace ya

tres años y por lo tanto pues nos parece conveniente introducir esta previsión por otra parte

en nuestra enmienda a que el gobierno vasco remita a

que consideramos que están sufriendo un importante retraso

dos reformas muy importantes y que eran compromisos de este gobierno en la anterior legislatura se puedan materializar a la mayor brevedad posible como es la remisión del proyecto de ley

de la inclusión social y también la reforma de lanbide con

pueda cumplir su finalidad de dar la empleabilidad de una forma efectiva a las personas desocupadas de alguna forma si no

exactamente tal y como lo recogíamos en nuestra enmienda a la totalidad sí se recoge la referencia a la remisión

del proyecto de ley de modificación de la ley del sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión que es un compromiso como digo

este gobierno y del que sabemos que ya hay un anteproyecto y por otra parte otro de los puntos de la enmienda de transacción hace referencia

los parlamentarios saben que esta ha sido una cuestión que esta parlamentaria la ha traído a esta cámara con bastante entusiasmo por lo menos los parlamentarios que estuvieron en la anterior legislatura y nos

absolutamente pertinente que se introduzca en ese sentido un punto específico para

de apoyo a las familias fuimos muy críticos en su momento con el retraso de las medidas implementadas y recogidas en el tercero plan de familia fuimos muy críticos también

se realizó más tarde de lo previsto fuimos muy críticos porque como decía muchas de las medidas de ese plan tercero plan de familia que hablaban de una convergencia con europa en el año dos mil veinte no se han

y lo que toca en ese sentido es que este gobierno y sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tienen las familias y el problema específico que tenemos en relación al reto demográfico que es una cuestión que hay que abordar y por la que le pregunté el otro día al lehendakari pues se haga un esfuerzo y ahora que se están elaborando los presupuestos se haga un esfuerzo en este sentido para apoyar a las familias en una situación

y además con bastante entusiasmo y en ese sentido bueno pues nos parece oportuno y estaremos atentos su inclusión y estaremos atentos

no me voy a detener en las otras cuestiones en los puntos porque ya las ha explicado la proponente pero solo quería decir que estaremos atentos a que este acuerdo

presidenta hoy debatimos en este punto sobre los datos de pobreza infantil reflejados en la encuesta de pobreza y desigualdad social que se realizó entre junio y noviembre del dos mil veinte y que fue

de este año por la consejera de igualdad justicia y políticas sociales la señora beatriz artolazabal

bianual y es importante destacar que dentro de la misma se señala que los índices de pobreza y bienestar en euskadi han mejorado

los índices específicos reales a la pobreza real han mejorad relativos a la pobreza real han mejorado

a todos los grupos sociales eso es un dato positivo y es importante ponerlo en valor y también se recoge que se ha incrementado la desigualdad pero no derivado por un empobrecimiento de las personas porque las personas más favorecidas se han enriquecido más estos son los datos recogidos en esta encuesta y que desde luego ponen

que teniendo en cuenta los efectos que ha tenido la pandemia del covid diecinueve es claro que las medidas adoptadas desde el gobierno vasco

los efectos negativos de la misma han surtido efecto y han servido como muro de contención paliando esos efectos sociales de esta crisis sociosanitaria medidas como los complementos

la flexibilización en el pago de la renta de garantía de ingresos el aumento de las ayudas de emergencia social

la puesta en marcha de programas sociales contra la pandemia mejoras graduales de las prestaciones económicas por hijos e hijas a cargo

de las familias con rentas más bajas el programa

iniciado en el confinamiento y que se sigue manteniendo para conseguir reducir la brecha digital en educación primaria y secundaria en centros públicos y concertados entre otras muchas de las medidas adoptadas la consejera de igualdad justicia y políticas sociales en su intervención en el pleno de control cuando se debatió la interpelación que ha dado lugar a esta moción ya puso de manifiesto estas diferentes medidas

y no voy a entrar a explicarlas más aquí hoy en este punto pero si no hubiera sido así el índice de pobreza real no hubiera disminuido de un seis coma uno por ciento en dos mil dieciocho

a pesar de que la encuesta se ha realizado en plena pandemia baja también el porcentaje de hogares que no cubren gastos básicos

y también han descendido las familias que se consideran pobres o muy pobres

en bi mila hogei la tasa de pobreza grave

era del cinco coma uno y estaba por debajo de la media europea que en ese momento era el seis por ciento por primera vez desde el dos mil ocho se ha reducido

eso es una evidencia algo se habrá hecho bien digo yo a nivel estatal y a nivel de comunidad autónoma pero a pesar de todo hay que seguir tomando medidas

para conseguir reducir los efectos de la pobreza y la desigualdad y seguir avanzando en cohesión social no obstante es necesario destacar que los efectos sobre los más vulnerables entre los que podemos destacar el caso de familias

a pesar de que hemos podido parar el golpe sufrido por la pandemia hay que tenerlo en cuenta pero esa situación no es nueva con la pandemia ya se ha puesto de manifiesto en anteriores debates en esta cámara por eso hemos defendido

políticas de protección para estos colectivos más vulnerables que eviten que puedan caer en una situación de pobreza extrema y eso porque también según datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales

que no consiguen salir de la pobreza a pesar de acceder a un sistema vasco de protección social

la ayuda de emergencia social la prestación complementaria de vivienda y ahora el ingreso mínimo vital estos datos son los que se tienen que tener en cuenta para seguir trabajando y adoptando medidas para reducir la desigualdad pero es evidente que esas cifras son el resultado de todo el esfuerzo realizado la pandemia así como también durante las políticas y el esfuerzo realizado en estos últimos treinta años y esos compromisos han sido plasmados dentro de la enmienda transaccional que hemos firmado el grupo nacionalista vasco

vascos con el grupo elkarrekin podemos y entre esos compromisos se recogen también referencias a leyes en las que ya se está trabajando la ley de derechos de la infancia y la adolescencia o la reforma del sistema vasco de garantía de ingresos señora gonzález en nuestra enmienda no hay inmovilidad de hecho dentro de esta enmienda transaccional se recogen

y presentamos en la enmienda a la totalidad el grupo nacionalista vasco y socialista vasco y hemos completado con un trabajo conjunto con aportaciones también efectuadas por el grupo elkarrekin podemos el resultado desde luego creo que es

compromisos con el esfuerzo conjunto de los tres grupos parlamentarios que enriquecen y pueden servir para adaptar esos compromisos y seguir mejorando y en esta línea ha hecho referencia no voy a entrar

ya los ha explicado la señora gonzález pero sí voy a hacer referencia respecto al último cuarto punto donde nosotros recogemos

el compromiso de que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que en la ley del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión

y especialmente para los menores nosotros hemos querido que se quede así es un compromiso amplio tenemos ahora el proyecto de reforma

el sistema vasco de garantía de ingresos yo creo que a través de esta proposición no de ley no se tienen que incluir ningún punto más que pueda implicar o que tenga que ver

los diferentes grupos parlamentarios podrán proponer en ese momento las

pero nosotros no creíamos que este es un momento donde meter un puntito de reforma del proyecto no el proyecto está ahí y señora garrido está en tiempo todavía porque el compromiso adquirido por el gobierno vasco

por la vicelehendakari señora mendia es de traer ese proyecto a esta cámara antes de

ese compromiso está ahí también se asumió el compromiso de la reforma

sus puntos tercero y cuarto creo que ya es un compromiso asumido por esta cámara en varias

y a nosotros nos parecía reiterativo a la hora de meterlo o añadirlo porque ya lo hemos asumido y ya lo hemos recogido

en otros casos y luego respecto a sus primeros dos puntos señora garrido yo creo que están incluidos dentro de los puntos que se han metido dentro de la enmienda transaccional incluidos un poco su intención y lo que usted planteaba dentro de los mismos aunque no recoja literalmente la expresión que usted recogía dentro de estos con lo cual agradezco que vayan a votar a favor porque creo que además esos dos puntos coinciden

con las aportaciones que ustedes presentaban en la enmienda a la totalidad el grupo eh bildu no ha presentado ninguna enmienda pues veremos cuando intervengan cuál es su posición

aurkeztutako mozioaren zioak dio como consecuencia del debate mantenido y en reconocimiento a la iniciativa y trabajo realizado desde la organización

en la promoción de políticas públicas efectivas en la lucha contra la pobreza infantil proponemos la siguiente moción guztiz ados

eta la consejera dijo anunció la puesta en marcha de un proyecto piloto de atención integral a menores víctimas de abusos sexuales y en palabras de la señora artolazabal después de todo un año de trabajo por parte de save the children y de equipos técnicos e institucionales dentro de un mes daremos un nuevo paso adelante hau elkarlanaren beste adibide bat da

mozioan zergatian esaten da como consecuencia del debate mantenido con la consejera de igualdad la señora

izan zen gure erkidegoko errealitatean oinarritutakoa su respuesta teniendo en cuenta el tiempo que disponía fue amplia y basada

forma parte de la base de esta moción datos que se pueden comprobar los datos son los que son y los reconocimientos internacionales también por algo será esto no quiere decir que el margen de mejora existe por supuesto está el departamento y en ello está todo el gobierno y las demás instituciones hay que mejorar las familias durante esta pandemia y todavía lo están pasando mal necesitan ayuda necesitan ayuda económica por supuesto necesitan ayuda psicológica pedagógica necesitan incluso refuerzo escolar baina

la incidencia de la pobreza real vuelve a retomar una línea descendente todos estos datos son de la encuesta a la que se hace mención o la que es la base de la moción caída de las carencias en el acceso a equipamientos básicos caída de las carencias en el acceso a internet

de privación material caída de la proporción de personas en hogares que no cubren las necesidades básicas los indicadores de problemas de alimentación también mejoran

mínimo caída de los indicadores de ausencia de bienestar mejora de los indicadores de capacidad de ahorro y de acceso a bienes o servicios de consumo como he dicho todos estos datos nos indican una tendencia hacia el polo de bienestar en la sociedad vasca datu hauek bi mila hogeiko pobreziaren eta gizarte

ze datuak frogatu egin daitezke jarraitzen dut fuerte caída de la incidencia de los problemas de pobreza y precariedad encubierta sin embargo

ha empeorado la pandemia ha aumentado más la pobreza en familias monoparentales sobre todo en las monomarentales y en familias de origen extranjero

sendotu egin da la señora consejera explicó que desde el departamento de igualdad justicia y políticas sociales se está realizando un estudio sobre pobreza infantil y se está comenzando a diseñar un programa de garantía infantil que integre la lucha contra la pobreza infantil en un marco

siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y de la menor todo esto está en la base de los programas y ayudas para la infancia y adolescencia que diseña e implantar

las situaciones en las que el gobierno produce unas encuestas pero cuyos resultados no afectan en absoluto a las políticas públicas incluso cómo se hacen lecturas de datos totalmente políticas e interesadas que no sirven más que para salir en la foto aunque la foto tenga poco que ver

como pasó por ejemplo en la última presentación de los datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales intervino la consejera de igualdad justicia y políticas sociales la señora artolazabal y realizó una valoración política

aunque su impacto el impacto de estas políticas no solo no se había medido ni había sido objeto de análisis al realizar la encuesta

en algunos casos no coincidía con la puesta en marcha de algunos de esos mecanismos como era por ejemplo la implementación

pero bueno eso parece que no importa que todo vale si te hace

los referidos por ejemplo al incremento de la pobreza infantil que motiva esta interpelación

parece que si uno no los menciona pues igual nadie se da cuenta

y no se empieza a cuestionar el porqué de esos datos la efectividad de algunos programas planes o pactos azkenean uste dut

porque miren en mayo de dos mil diecisiete se presenta el documento de bases para la reforma de la renta de garantía de ingresos

que la rgi ha resultado menos efectiva para reducir la pobreza infantil

la situación de la infancia en euskadi en términos generales es buena

pero que esa mejor situación comparativa no impide señalar y destacar todos aquellos aspectos preocupantes que se plantean en relación a las familias y a la infancia en el actual escenario socioeconómico

el desarrollo de las actuaciones que se derivan de este plan o sea que actuar en este sentido está justificado y hay que analizar si lo que

y entre otras dificultades se menciona que persiste el diferencial de pobreza asociado a la presencia de niños y niñas en el hogar se señala que la pobreza en euskadi tiene un perfil inminentemente infantil y juvenil que detrás del crecimiento de la pobreza infantil se esconde un crecimiento de la desigualdad dentro del propio colectivo

y que crece la preocupación por las dificultades para la movilidad social y por la reproducción intergeneracional de la pobreza eta horregatik planak ardatz nagusi bezala dauka

a la señora garrido le quería decir que respecto a la inclusión o no de aspectos

entendemos como le he dicho al inicio que algunos sí están contemplados en la transaccional y agradecemos el apoyo que ha manifestado hacia la misma aspectos como el del interés superior

o el primer punto de su enmienda que está integrado en los objetivos y enfoques que la recomendación de la unión europea establece para la implementación

pero por otro lado también quería decirle que mientras desde su grupo parlamentario sigan insistiendo en el eje empleabilidad inclusión social y siga siendo un principio

están errando en el enfoque cuando es un suelo común

no esté únicamente ligado a la condición de empleabilidad de las personas y en cualquier caso cuando el mercado laboral encima no es garante per sé de la reducción de la pobreza infantil

el apoyo a la enmienda transaccional a la señora sánchez pues este parlamento es que no puede conformarse en que las pnl que se aprueben consistan en esperar

como hasta ahora como si no tuviéramos elementos de evaluación presentes

o incluso a dar una respuesta adecuada e integral al bienestar de toda la infancia en la comunidad autónoma ni usted misma lo ha señalado hay personas que siguen quedándose fuera del sistema de protección social las políticas sociales no se miden al peso sino en términos de calidad y en si sirven o no para el fin que fueron creadas señora juez bueno

que el liderazgo común el trabajo comunitario el auzolan a la hora de reforzar y orientar la acción del gobierno en la lucha contra la pobreza infantil debe partir de la base

en compromisos a pie de calle en compromisos reales creo que desde nuestro grupo sí demostramos que cuando hacemos una propuesta la hacemos muy aterrizada muy concreta los datos ahí están como ha replicado

quiero agradecerle sinceramente es verdad que hemos tenido

con los textos de más arriba más abajo unas palabras otras y bueno

que cuando se llega a un acuerdo transaccional se menciona pero no se dice pero

insistimos este es el acuerdo al que nos han permitido llegar es un paso necesario pero no es la marcha o ritmo a la que nos hubiese gustado

a caminar como he dicho antes paso a paso seguir haciendo el trabajo que nos toca a nosotras desde la oposición sabemos cuál es

es necesario encontrarse en puntos intermedios y yo creo que nos hemos encontrado en un punto intermedio del que seguro se pueden beneficiar muchos

a los grupos que apoyan al gobierno señalarles que la referencia

que hay un compromiso de remisión con un plazo concreto de aprobarse en el consejo de gobierno antes de una fecha está ahí obviamente

que es el compromiso adquirido pero también la pasada legislatura hubo compromisos en relación a este proyecto de ley y otros que no fueron remitidos y por eso creo que es importante

a poner en un texto como ha considerado en esta ocasión el grupo que represento de nuevo

pero si uno repasa los objetivos que se señalan en relación a lanbide es la empleabilidad y desde luego nosotros

y que las ayudas sociales hay que dárselas a las personas obviamente cuando lo necesitan y hay muchas personas que lo necesitan por el tiempo que lo que necesitan pero el fin último de un sistema de protección tiene que ser la empleabilidad y dar una oportunidad a las personas

y de tener un trabajo y creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad y desde las administraciones públicas

además lanbide está muy claro cuáles o son sus objetivos sus fines en ese sentido

empleabilidad de las personas desocupadas de las personas que no tienen un empleo reforzando todos aquellos mecanismos que se han demostrado que no son efectivos en áreas como la intermediación la orientación

y nosotros vamos a seguir siendo exigentes porque creo que ese es un reto que tiene el gobierno vasco y sobre todo en una materia en la que tiene competencia exclusiva y por lo tanto es una herramienta fundamental para ponerla como decía al servicio de la empleabilidad de la ciudadanía vasca

pandemia pues sus consecuencias se están notando obviamente en el mercado laboral y especialmente cómo no en los jóvenes vascos besterik gabe eskerrik asko

desde el escaño muy brevemente señora

la renta de garantía de ingresos usted ha señalado no ha sido suficiente por sí sola para eliminar

pero es que la renta de garantía de ingresos no es la única herramienta con la que contamos dentro de nuestro sistema de protección tenemos otra serie de medidas he puesto de manifiesto muchas de esas medidas

ahora tenemos el ingreso mínimo vital se cuentan con diferentes herramientas que todas suman

la renta de garantía de ingresos y yo quiero

que no fue responsabilidad del gobierno el no llegar a un acuerdo no no fue responsabilidad del gobierno no llegar a un acuerdo en la anterior legislatura

para la reforma de la renta de garantía de ingresos estuvimos dos años intentando negociar con ustedes y no hubo forma de poderlo

adelante entonces no echen balones como si fuera la responsabilidad del gobierno vasco el que no saliera esa reforma porque fueron ustedes los que estuvieron retrasando y no permitieron la posibilidad de poder llegar a un acuerdo ahora estamos en otra legislatura se ha producido una modificación intermedia que es la aprobación del ingreso mínimo vital que se ha metido también dentro de esta reforma del nuevo proyecto del sistema de reforma de garantía de ingresos y para la inclusión como no puede ser de otra forma porque tiene que entrar incluirse dentro del mismo y eso ha conllevado también una serie de modificaciones importantes dentro del nuevo proyecto

como he indicado también se va a cumplir el compromiso está sobre la mesa

de ponerse a trabajar de presentar las enmiendas que consideren para mejorar el proyecto y que salga cuanto antes en beneficio de todos los ciudadanos

para finalizar simplemente agradecerle

creo que es una enmienda que suma que recoge una serie de compromisos importantes y amplios en diferentes materias que sirven

en el buen camino como todos queremos nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak juez andrea zurea da hitza bertatik

muchas gracias señora presidenta buenos días señorías y muchas gracias señor consejero

que tiene su origen efectivamente en una interpelación que hicimos la semana pasada en el que queríamos darle la oportunidad

dadas las noticias que estábamos viendo que hablaban de un acercamiento

que defendía la imposición generalizada del euskera y la integración en una única red de centros públicos y concertados eliminando de esa forma la posibilidad de elección del modelo educativo por parte de los padres lamento decirle que su respuesta no nos pareció

las dudas que habían provocado la interpelación y por ese motivo

esta moción que de facto constituye una segunda oportunidad

cuál va a ser el enfoque en el que están trabajando en la próxima ley de educación especialmente en estos dos importantes temas la imposición del euskera y la red concertada y aunque ustedes nos acusen repetidamente de generar conflictos artificiales de generar confusión en la ciudadanía y de querer asustar supongo que se refiere a sus votantes

no lo hemos levantado nosotros sino que está en la sociedad vasca y que la prensa se ha hecho eco de ello como muestra y solo para combatir la mala memoria le voy a recordar algunos de los artículos o algunas de las apariciones que han salido al respecto

el uno de agosto el correo sacó el artículo que tituló más horas de lengua que la media española y peores resultados el doce de septiembre el correo da a conocer un informe

el catorce de septiembre el gobierno responde a la noticia de el correo pidiendo fomentar el euskera fuera de las aulas ante el fracaso del modelo quinientos el mismo día el mundo titula educación gasta

un cuarenta por ciento menos que para la pública el diecinueve de septiembre el correo vuelve a la carga y realiza un examen al modelo quinientos el mismo día crónica vasca también entra en el tema los tres modelos se quedaron en uno entre comillas el mismo día diecinueve bildu presentó su modelo de ley de educación eliminando la concertada y con inmersión lingüística el veinte de septiembre

que la concertada no estaba en peligro pero calló sobre el español el veintiuno de septiembre hubo un debate sobre educación en radio euskadi en el que el portavoz del pnv

a comillas limar aristas con bildu el veintitrés de septiembre otegi pidió al pnv un pacto de estado en educación el veintiocho de septiembre

el mundo tituló se da a conocer que el gobierno vasco usa aulas solo en euskera para integrar a los niños extranjeros por tanto repito este debate

para asustar a sus votantes por mucho que lo repita o le irrite al señor bildarratz es un debate que como puede ver está en la calle

y es lógico y legítimo que yo lo traiga aquí y no se empeñen en decir que no somos constructivos

para demostrarlo empezaré diciendo que hay algunas cuestiones básicas tres en concreto

en base a las palabras del consejero de educación en la última interpelación estamos de acuerdo señor bildarratz en que la educación es el tema más importante de la ciudadanía sociedad porque representa el futuro de la misma lo hemos repetido muchas veces para un liberal como yo la educación está por encima de todo

también estamos de acuerdo en que la nueva ley de educación debería recoger las aportaciones de los expertos debería basarse en ellas que debe poner en el centro al alumno de acuerdo completamente y que debe tener muy en consideración

por supuesto principios básicos que compartimos todos como creo que no puede ser de otra manera pero también estamos de acuerdo en que la educación necesita evaluación mejora

estamos de acuerdo en estos tres puntos pero nos genera muchas dudas el hecho de que hasta ahora el gobierno

y nos alegramos de que pretenda rectificar en el futuro en el último pleno de control el señor consejero respecto a la educación concertada dijo textualmente que se reforzaría las dos redes

y espero que así sea respecto al tema de la obligatoriedad del euskera fue bastante menos claro

y que se respetará la libertad de elección de las familias son palabras que he cogido de la intervención

y espero que también esto sirva para todos los centros públicos la realidad es que hoy los padres no pueden elegir el modelo lingüístico en el que estudian sus hijos por mucho que usted repita lo contrario una y otra vez

que entiende cualquiera y que aquí hemos expuesto repetidamente la falta de oferta el noventa y ocho por ciento de los colegios públicos no ofertan el modelo a y si no hay oferta no nos engañemos

es escamotear la verdad a la sociedad vasca que sabe muy bien con los problemas que se encuentran en cada inicio de curso cuando intentan matricular sus hijos en español y ustedes lo justifican diciendo

y obtienen mejores resultados permítanme que no sea yo mismo

sino que vuelva otra vez a recurrir a la misma prensa a la que antes me he referido para que no me vuelva a acusar a mí de distorsionar la realidad

tres piezas de las últimas semanas para no aburrir a esta cámara más horas de lengua que la media española y peores resultados el modelo quinientos

alumnos bilingües la educación

el fracaso de tres modelos que se quedaron en uno así que por muchas veces que usted lo repita

mejores resultados sino peores mire no tiene

en relación al objetivo del euskera ya se lo dije el otro día según datos del isei el cincuenta y tres por ciento

cómo van a aprender los alumnos matemáticas o ciencias si no dominan la lengua en la que se les imparten

de cajón esta realidad es tan evidente

que no entendemos cómo puede mantenerse la mínima lógica es una realidad que viven a diario

consagrado a la misión nacionalista de imponer el euskera a todos a machamartillo y que lo que está provocando es que hoy el euskera

está teniendo cuotas de rechazo inéditas y cada vez que lo denunciamos

de forma prepotente y paternalista con permiso nos pide que cambiemos de actitud

pero no voy a dejar de denunciar esta injusticia porque legítimamente represento

que nos han elegido para traer su voz a este parlamento y no importa las veces que ustedes

o que seamos el único grupo que hace estos planteamientos porque seguiremos siendo

a las puertas de una nueva ley de educación coincido con ustedes en que es el momento de escuchar sin prejuicios

la transacción que hoy tendremos muestra su cercanía y su predisposición a pactar preferentemente con bildu bueno

porque hasta ahora no solo no se ha interesado por ellos sino que nos los ha combatido vehementemente y la cámara es testigo de esto y como ya hemos mostrado en esta cámara tenemos un gran número de aportaciones que hacer para esta nueva ley de educación que van desde un nuevo procedimiento transparente para que los padres puedan expresar sin presiones sus preferencias por la lengua de la educación de sus hijos

para reforzar la capacidad de profesores y claustros para poner orden en las aulas y en los centros sistemas de evaluación periódica del profesorado planes de selección y formación de profesores mucho más ambiciosos que los actuales inversiones para incrementar cuantitativamente y mejorar cualitativamente la presencia del inglés en la educación incremento de becas y ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades

medidas para reforzar la educación concertada recursos para reforzar también de forma sustancial la red pública inversiones para lograr la gratuidad universal de la educación infantil

la libertad del centro para implantar la jornada continua en función de su modelo educativo medidas para erradicar de forma

hasta medidas para garantizar la neutralidad democrática de los espacios educativos públicos

y debemos hacerlo de cara a la nueva ley de educación en la que ustedes tienen la oportunidad de demostrar hasta qué punto es verdad esa actitud de auzolan de escucha de consenso

y esperamos de ustedes una actitud tan abierta y dispuesta como la que han tenido con bildu si es verdad que quieren sacar una ley como han dicho consensuada

y que por lo tanto sea capaz de sobrevivir muchos años y muchos gobiernos porque señores del gobierno vasco con la educación no se puede jugar y todos sabemos que sacar leyes sin consenso sujetas a tensiones y a cambios continuos no solo no beneficia a la educación sino que la perjudica gravemente

un instrumento de implantación de ideologías partidistas sino la herramienta más valiosa que tenemos para construir un futuro de convivencia de modernidad de progreso y de democracia es una oportunidad

y estoy seguro de que en esto también estamos de acuerdo muchas gracias eskerrik asko gil jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna

buenos días bueno yo en primer lugar quiero agradecer esa enorme preocupación que la derecha liberal como se define el señor gil muestra por el tema de la educación

y de cualquier democracia probablemente la más importante de todas por desgracia en muchas ocasiones no ha sido así

y solo ha habido un momento en la historia democrática española reciente

en que con el pacto ya prácticamente cerrado el pp frustró en el último momento y no fue posible

por eso me parece muy importante el compromiso del consejero de que este proyecto de ley sea un proyecto con el mayor consenso político

numéricamente sería posible entre los miembros simplemente del gobierno partido socialista y partido nacionalista pero precisamente por la enorme importancia que tiene una ley de educación es importante conseguir el máximo consenso posible

independientemente de la importancia que usted le dé y yo también a hablar del modelo educativo nos parece que un pacto educativo no se plantea ni se soluciona a base de mociones ni de pnl en el parlamento esa no es la fórmula eso es una fórmula del regate corto

pero lo que se trata es de buscar un lugar de encuentro un lugar común en el que todos seamos capaces de volcar lo mejor de nosotros mismos por eso hemos presentado esta enmienda

a tramitar a discutir a acordar cuál va a ser de la educación de nuestros hijos e hijas cómo va a ser el modelo educativo qué pasa con los modelos lingüísticos cuáles son los mecanismos de participación a todos los niveles que se establecen

cómo se imparte cada uno de los idiomas qué efectividad tiene si realmente estamos cumpliendo los parámetros mínimos para tener una educación de calidad de todo eso

y le animo a que usted se sume también a ese esfuerzo por eso

propuesta concreta y nos parece mucho más importante que hoy mismo tomemos el acuerdo de que este parlamento

de esa ponencia que empiece a estudiar ya la nueva ley de educación y a eso queremos dedicarnos desde el día de hoy eskerrik asko pastor jauna

señor gil directamente y muy breve voy a decir que estamos en las antípodas en cuanto a política educativa se refiere y vamos a votar no a su moción

en la enmienda transaccional que se va a aprobar berri txarraken ikasten kantuak horrela esaten du ikasten akatsetatik ikasten

educativo de diferentes velocidades un sistema educativo segregador y esto como país es inaceptable no nos lo podemos permitir nuestro sistema

sobre todo y esto también hay que decirlo la segregación por lugar de nacimiento y la segregación socioeconómica y tenemos que acabar con esto antes de que sea tarde para evitar también una fractura social más allá de la fractura educativa eta hirugarren

loece lode logse lopeg loce

el reto del acuerdo educativo hemos abierto la posibilidad de alcanzar consensos firmes y amplios que definan las bases de la educación vasca para las próximas décadas la izquierda independentista estamos preparada para abordar el reto que tenemos enfrente y en euskal herria bildu aprovecharemos esta ventana de oportunidad

esta oportunidad este es el compromiso que tenemos con este país eta hezkuntza hitzarmena zertarako

más allá de artículos que poco aportan más allá de intenciones de distorsionar los discursos y las diferentes propuestas

quiero hacer un emplazamiento seamos rigurosas seamos rigurosos y trabajemos conjuntamente para transformar nuestro sistema educativo euskal herria bildu tenemos una propuesta la hemos llamado hacia un sistema educativo público soberano una propuesta

en la comunidad autónoma vasca con sinceridad con voluntad y con buena disposición daremos el resto daremos todo lo que tenemos para lograr un gran acuerdo de país garrantzitsua dena den

la sociedad vasca es consciente de que sobre todo con la educación nos estamos jugando

y sobre todo nos estamos jugando el futuro del país eta bete betean azpimarratzen ditut berba hauek esparru berri bat definitzeko gai

así se recoge en el marco actual de nuestra ley sí y se cumple y es que este gobierno ha trabajado siempre sigue trabajando y va a seguir trabajando para garantizar ese derecho conforme a la ley euskal hezkuntza sistema

silenciadas que no pueden ejercer su derecho de elección cómo puede ser que siendo así esa situación

pues no lo entiendo no lo entiendo no

begirada zintzoa eta egokia behar izango duelako tenemos que estar para escuchar para debatir y tomar en consideración

de las personas expertas en materia de educación ondorioz garrantzitsua da etorkizuneko hezkuntza sistema eraikitzeko

con euskal herria bildu pero también con usted estamos dispuestas

de la cámara y un debate además de trazo grueso sobre elementos nucleares del sistema educativo vasco una iniciativa que con todo el

la ha querido ilustrar con recortes de artículos de los medios de comunicación ha mezclado

con el idioma con el refuerzo de la concertada y con una supuesta desventaja que da un idioma para adquirir competencias

propuesta va a recibir un no rotundo por parte de elkarrekin podemos izquierda unida por coherencia y por responsabilidad

del refuerzo de la educación concertada en euskadi dónde y en euskadi

de europa con mayor educación privada concertada lo hace además en un sistema con un sistema en euskadi de

ocasiones no ha dicho usted nada de esto se convierte en un sistema de selección del alumnado ese sistema de admisión y de selección el tercer índice de segregación escolar por origen y por clase más alto del estado español y uno de los más altos de la unión europea ustedes se llenan la boca con la palabra libertad como si además les perteneciera a ustedes la libertad sin igualdad no sirve absolutamente para nada

sin igualdad solo sirve para que los aventajados puedan elegir y los desaventajados se queden con las migajas usted

liberal un pensador liberal isaiah berlin decía qué es la libertad para aquellos que no pueden usarla sin las condiciones adecuadas para el uso de la libertad cuál es el valor

su visión de la libertad es mantener los privilegios de unos pocos esa es su visión

eta era mediatikoan ez dugulako parte hartu no hemos participado de este proceso que se ha llevado

principales del cóctel que estaban negociando entre el partido nacionalista vasco y euskal herria bildu hasta ahora

y vamos a ver lo que podemos cambiar para saber si vamos a estar participando

no es una cuestión de celos ni siquiera es una cuestión

en euskadi en las últimas semanas vamos a participar porque la educación en euskadi afronta unos retos unas ventajas

nuestro papel y el papel que le toca a elkarrekin podemos izquierda unida en este debate horrexegatik parte hartuko dugu

no puede sorprender a nadie porque el gobierno aprobó un calendario

y un calendario y en esas claves estábamos trabajando no solo nuestro grupo parlamentario sino como ustedes saben el conjunto de los agentes de la comunidad educativa

sorpresivamente o no el lehendakari anunció que se adelantaba el proceso de debate de la ley de educación nos causó sorpresa puede ser improvisación no lo creemos midió el lehendakari y el consejero de educación la repercusión de un debate

la opinión pública tampoco lo sabemos no nos gustó y nos pareció irresponsable la forma de hacerlo kuriosoa izan zen ere bai

vamos a tener el espacio de la ponencia para escuchar para aprender para incomodarnos ante la realidad también del sistema para sorprendernos y para felicitar también algunas de las buenas prácticas que por ejemplo ya se han citado en una intervención anterior del sistema educativo vasco desde elkarrekin podemos estamos dispuestas pero también alertamos que nadie tenga prisa en cerrar un acuerdo

por debates incómodos que nadie tenga miedo a mancharse que nadie tenga miedo a abrir las puertas de esta ponencia a la sociedad a la comunidad educativa esta ponencia no puede ser una ponencia de los grupos parlamentarios que estamos representados en esta cámara o no solo tiene que contar con la comunidad educativa con la participación y con la co construcción de la comunidad educativa si no esta ley será una ley sin mucho futuro eztabaida

baina erroetatik eta erradikala radical de ir a raíz de los

pero aspiramos con humildad a transformarla no negamos la existencia de la red concertada en euskadi existe

lo que exigimos es que cumpla que asuma la diversidad social y educativa que tiene euskadi y que además si no cumple no pueda recibir fondos

egin behar dugu por tanto tranquilidad propuestas debates abiertos análisis de los problemas

bueno ya lo hemos visto todos creo que el debate es una magnífica

nos encontramos por una parte al partido socialista y al partido nacionalista vasco pidiendo consenso y diciendo que quieren pacto

pero luego solo acuerdan con bildu y aquí está la transacción que vamos a ver la transacción la firma con bildu

eso que dicen de las puertas abiertas de escuchar de integrar todo de hacer una ley de pacto de verdad la pregunta es

a cambiar algunas cosas con las que a lo mejor no están de acuerdo ustedes

o todo esto son solo palabras bonitas esto el tiempo nos lo dirá pero ya estamos viendo cómo son las cosas

que tenemos posiciones completamente contrarias en las antípodas de la educación esto como titular está bien y además no me escandaliza la verdad es que

no aspiraba a lo contrario le diré que sinceramente creo que no es cierto

creo que hay otros muchos que no lo hemos visto estos días en la comisión de educación no estaba usted en las antípodas respecto al tema de

se colocan ahí la pregunta es entonces

la ley la imposición de su punto de vista es decir ninguna ningún tipo de negociación porque claro

si ya han presentado en público sus conclusiones ustedes ya han presentado el modelo

nada o a abrir nada pues esto no es exactamente lo que estábamos diciendo y me temo que esto es lo que va a ocurrir es decir hay cuestiones en las que estamos

pero no veo la actitud de acuerdo real

no ha habido esa predisposición al consenso realmente bueno respecto a la ponencia bueno ya saben ustedes que yo personalmente no soy muy partidario de ponencias porque pienso que es una magnífica forma de dar una patada al balón para adelante y de perder el tiempo y el dinero pero en este caso

ninguna mala idea y de hecho vamos a votar abstención no nos parece mal porque creemos que se ayuda a la reflexión se ayuda a que se incorporen más puntos de vista y tal puede estar bien bueno me preocupa

que esta ponencia salga como una demostración más de que efectivamente

a bildu y por esa razón decía no la vamos a votar afirmativamente votaremos

esta actitud de consenso esta actitud de escucha y de integración

con la capacidad de integrar también nuestro punto de vista que son tan legítimos como cualquier otro aunque no les guste

habla usted de imposición euskal herria bildu lo único que ha hecho es prepararse para esta maratón creemos que en educación

creemos que hay que andar el camino creemos que tenemos que hacer un proceso para llegar a acuerdos

con sus bases y con la opinión pública y con la opinión educativa

hacer una propuesta una propuesta porque no tenemos miedo al debate y vamos a encarar el debate

esta propuesta que en esta cámara tiene el aval de veintiuno parlamentarios y parlamentarias y solo conozco de momento en este parlamento una propuesta y es la que ha hecho euskal herria bildu

las propuestas que el resto de grupos van a traer a esa comisión a esa ponencia pero insisto de momento una propuesta integral única y exclusivamente la ha hecho euskal herria bildu esperemos que la ponencia dé

opiniones y todas las propuestas estén encima de la mesa e insisto de imposición nada lo único que pretendemos es marcar

verá que esos temas son los que también muchas otras veces hemos debatido en la comisión de educación hablamos de descentralización hablamos de la autonomía de los centros hablamos del papel que tienen que jugar los ayuntamientos en el sistema educativo

lengua de aprendizaje de las lenguas hablamos de poner al alumnado en el centro y hacemos un diagnóstico bajo nuestro punto de vista sincero sobre lo que es hoy en día nuestro sistema educativo por lo tanto imposición ninguna pero ante seis parlamentarios y parlamentarias del pp ciudadanos veintiuno de euskal herria bildu por lo que dejemos hablar a la ciudadanía dejemos hablar a la comunidad educativa lleguemos a consensos pero que una minoría no imponga a una mayoría de este parlamento su relato hau esanda akordioari dagokionean

es usted quien ha favorecido la creación de esta ponencia presentando la iniciativa que ha presentado

una y otra vez apela a la futura ley de educación y sabe tiene claro

lo hemos dicho todos los grupos que previa a esa ley lo que toca

el pacto el acuerdo de educación previo es por eso que cuando planteamos presentar una enmienda

no cabía otra posibilidad que presentar esta enmienda que hemos terminado presentando el problema en este caso lo tendría usted porque es usted

nosotras estamos dispuestas a acordar en todo momento bajo cualquier circunstancia con el grupo que sea cuando entendemos que es bueno y necesario para nuestro país

toda hablaba del tiempo el tiempo lo dirá y como ya hemos mencionado a berri txarrak varias veces durante esta intervención berri txarrak también tiene otra bonita canción que dice

y al señor martínez sí que me gustaría decirle porque comentaba que nos abstenemos porque no hemos participado

lo que ha dicho euskal herria bildu tiene su propuesta lo ha presentado no es nuestra propuesta no es la propuesta del partido nacionalista vasco cada uno la suya este es el proceso hoy empieza el proceso aquí se abre el proceso se abre un espacio de debate de reflexión de escucha

las bases del sistema educativo vasco del futuro hoy empieza aquí el proceso por tanto le animo a que vaya más allá bienvenidos sean seamos todos y todas y espero que mis niveles de estrógeno ayuden

la transacción pero hemos dicho que vamos a votar que sí que vamos a participar y hemos explicado también algunas

dejar eso claro no tengo ninguna otra cita de berri txarrak para poner

encima de la mesa pero vuelvo a decir una ponencia hoy puede ser que acabemos como de buen rollo

esta transacción y esta votación pero en la ponencia va a tocar

y va a tocar escuchar cosas muy incómodas y va a tocar ponerle soluciones desde elkarrekin podemos izquierda unida lo hemos dicho en más de una ocasión y tenemos nuestra propuesta educativa aunque no hayamos

está en las quince resoluciones que presentamos también en el año dos mil dieciocho

ahí están y tendremos lógicamente que modular y que cambiar y que acordar y para eso estamos dispuestos y dispuestas pero lo decía antes zintzotasunez

andreari eta baita zuri ere koldo andrea bienvenida a la tierra de tus antepasados ongi etorri etxera y ongi etorri también a este parlamento la representación

de una parte de euskal herria esto es lo que somos con nuestros claros y con nuestros oscuros

euskera catalán valenciano gallego aranés astur leonés o aragonés son algunas de las lenguas oficiales reconocidas por los diferentes estatutos de autonomía pero también están el rifeño o tarifit el árabe el romaní

y es que en europa a día de hoy se calcula que alrededor de cuarenta millónes de ciudadanos utilizan regularmente una lengua regional

nuestra sociedad por lo tanto es una sociedad atravesada por la diversidad lingüística que es a su vez una manifestación fundamental de la diversidad cultural lengua y cultura están ineludiblemente ligadas y es en la medida

estaremos defendiendo la segunda la sociedad vasca en particular

cuestión ya que desde hace tiempo estamos inmersas en la tarea de darle al euskera el valor que se merece y el de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía vasca no obstante y pese a los esfuerzos que las instituciones y la sociedad en su conjunto dan por impulsar el conocimiento y el uso del euskera esta sigue estando en una situación de gran vulnerabilidad

y hoy concretamente en el entorno audiovisual es uno de los más importantes

pues si tuviéramos que resaltar los hitos históricos en este cambio de siglo que hemos vivido para mí sin duda la importancia que las comunicaciones han adquirido a raíz del desarrollo de internet y de las tecnologías de la información

mientras casi la totalidad de comunidades autónomas cuenta con una corporación pública de radio y televisión española

bastante importante estas son a su vez cada vez menos demandadas en especial por la juventud que las ha abandonado

el avance la importancia que la cultura audiovisual ha tomado hasta tal punto que hoy en día es inconcebible el ocio las relaciones sociales

el avance tecnológico en materia de comunicación ha traído consigo una serie de cambios sociales de no menos importancia

al mismo tiempo que las viejas formas de ver televisión se han quedado obsoletas

con la paradoja de que los grupos sociales más euskaldunizados y por tanto los que deberían liderar el cambio y tirar del carro

menos euskaldunizados y donde la influencia además de la administración es menor evidentemente ante estos nuevos retos como

se requieren nuevas medidas por parte de los poderes públicos son imprescindibles medidas

o medidas que aseguren el derecho a una información veraz plural y contrastada

que nuestra lengua y cultura también ha de estar presente en este espacio

absolutamente central y es por ello que desde nuestro grupo en el congreso también están incidiendo en el plazo legislativo en este sentido

en el marco del debate y de las conversaciones que se mantienen en torno

nuestras posiciones son claras y apostamos firmemente por la defensa y la garantía de la diversidad lingüística a día de hoy el anteproyecto de ley no es definitivo y si esto es así es por la voluntad de unidas podemos

estas cuestiones nos preocupan mucho y por eso desde nuestro grupo se impulsó ya en abril una proposición no de ley que entre

por un lado la apuesta por los contenidos en los canales de televisión y en las plataformas digitales

es decir doblaje subtitulación y autoaudiodescripción en las lenguas oficiales y también en las propias

por supuesto en euskera y por otro lado la de garantizar al menos el treinta por ciento de los contenidos

de las producciones sea en lengua oficial o propia diferente al castellano

pese a todo lo anterior en elkarrekin podemos izquierda unida creemos que en euskadi podemos ser más ambiciosos y debemos apostar

para que el euskera ocupe el espacio en el ecosistema audiovisual que se merece

con las nuevas previsiones legislativas que son necesarias sin duda y de hecho podríamos mirar a otras comunidades autónomas que en ese sentido ya las tienen legisladas desde nuestro grupo parlamentario creemos que hay que hacer hincapié y es el momento

puede y debe hacerse a través de e i te be deben darse los pasos necesarios para implementar esta nueva forma de ver televisión ya va siendo hora de que desde la administración se ponga en marcha

donde muchos creadores y creadoras vascas puedan mostrar sus obras y desde esta misma plataforma se garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía o vamos a dejar

el desarrollo comunicativo en euskera y qué pasa con las personas que no pueden permitirse

plataformas de pago desde nuestro grupo parlamentario lo tenemos claro

y la que lidere la difusión audiovisual motor no solo de la creación sino también del impulso socioeconómico

asimismo al tiempo que reconocemos el papel que e i te be debería cumplir en todo esto es necesario también repensar las condiciones en las que se realiza

la serie esta coreana

para subtitularla ha sido toda hecha de una forma automática por un programa de ordenador

están reclamando condiciones justas de trabajo y justo ayer también leíamos sobre lo agónico de la situación

es el momento de revertir esta situación y también hay que pedir más inversión pública

quiero subrayar dos cuestiones que hemos ya que ya he comentado anteriormente desde elkarrekin podemos izquierda unida tenemos claro nuestro compromiso con la diversidad y los derechos lingüísticos la semana pasada trajimos

sobre era muy amplia sobre el euskera hoy hemos alcanzado este acuerdo en materia audiovisual

en los diferentes medios audiovisuales y también creemos que debemos ampliar el marco y abordar el debate de las necesidades

no solo desde el ámbito competencial hay que reflexionar en torno al papel de e i te be

aunque hemos hablado específicamente del sector del doblaje nos consta que el resto de

escuchándole he tenido que volver a mirar las firmas de la moción porque sinceramente me han entrado dudas no sé si en este rato se ha arrepentido usted de la moción o no pero de verdad

esa moción hace escasamente una hora no quizá sean diferentes formas de caracteres a mí me gusta más subrayar la parte positiva no yo creo que siempre lo he hecho aquí

el subrayar aquello que nos están uniendo no y luego siempre tendremos tiempo de poder perfilar y pulir aquello que nos separa no por eso antes se lo comentaba en privado que me daba apuro porque mi intervención iba a ser un poco corta porque realmente volver a hablar de aquello

subrayar la gran importancia del sector audiovisual pues bueno lo ha hecho usted también lo ha hecho el señor angulo yo creo que posiblemente sea la mayor herramienta que ha tenido

desde el siglo veinte para generar pensamiento para generar identidades para generar un ideario colectivo es una herramienta potentísima y así la hemos venido utilizando con todo lo bueno y con todo lo malo que ello conlleva no podríamos poner como ejemplo pues bueno desde la reescritura de la historia de la ocupación de norteamérica en enclave de superhéroes de vaqueros

es realmente importante no otro ejemplo por ejemplo estoy convencido de que por mucho que discutamos en este foro

pasado más reciente de este país el pasado que nos ha tocado vivir en la importancia que va a tener en el ideario colectivo películas como maixabel

van a ser realmente más importantes o con mayor calado insisto nos guste o no

por otro lado también en alguna comisión que usted preside he tenido

sobre las plataformas y la cohabitación entre las culturas más minoritarias llamémosles así las lenguas más minoritarias y estas grandes plataformas que desgraciadamente desde mi punto de vista vienen para quedarse no porque

muy difícil y problemático y sobre todo por una vez más por esa idea de construcción de ideario y sobre todo de homogenización de ese ideario

muchas de estas plataformas también he de decir que otras plataformas como puede ser el caso de la española filmin está haciendo un trabajo extraordinario impulsando el cine nacional tampoco quiero meter en el mismo saco

efectivamente en el anteproyecto de ley del que ha hecho usted tanta referencia en su intervención y perdone que me dirija

la promotora de esta iniciativa está todavía en una fase de estudio de hecho

no ha querido presentarlo al consejo de gobierno y yo creo que es de sobra conocida la sensibilidad del señor iceta las lenguas cooficiales del estado entonces en ese momento todavía está en un proceso de estudio y elaboración antes de pasar por el consejo de gobierno pero sabe usted perfectamente que después se abrirá la etapa de de trámite parlamentario en el que los grupos y su grupo últimamente está demostrando saber influir y saber incidir en la política también nacional tendrá su oportunidad como el resto de grupos y de la manera y la forma que hemos llegado hoy aquí a un consenso yo creo que un consenso atrevido y que creo es de su agrado

y me gustaría que ese mismo consenso pudiera llegarse

de esta ley audiovisual por tanto simplemente y para terminar agradecer la valentía y el esfuerzo y la generosidad de los diferentes portavoces o los diferentes representantes de los grupos la primera usted señora agirre

que hasta hace poco hemos estado trabajando para intentar integrar su enmienda en la transaccional al señor díez cómo no también por el trabajo que hemos venido realizando yo creo que

tenemos que proteger lo que es nuestro tenemos que proteger aquello

por ser un pueblo pequeño es más delicado y más frágil y desde luego yo creo que tenemos que protegerlo con amplios consensos sea aquí o sea en el congreso de los diputados allí donde nos toque nada más muchas gracias

es una realidad que no es ni buena ni mala es una realidad y es una realidad

una realidad que nos exige adaptar las normas de las que disponíamos hasta ahora y que fueron creadas o que fueron adoptadas para regular otros contextos otras realidades con respecto al mundo audiovisual y nos exige adaptar nuestro sistema normativo a los nuevos tiempos no ya solo

estamos en el año dos mil veintiuno tercera década ya del siglo veintiuno

estas nuevas normas que adoptemos van a tener que cambiarse posiblemente en un periodo no demasiado largo de tiempo porque estamos hablando realmente cambiante y volátil y creo que tenemos que ser conscientes de que es posible que dentro de no demasiado tiempo nos vayan a volver a exigir cambios normativos y bueno en ese proceso de regulación es en el que están las instituciones por un lado la unión europea una directiva que ahora a los estados miembros deben transponer y por otro lado también lo está el gobierno del estado que ha elaborado un anteproyecto de ley

hoy aquí y nosotros tenemos que reconocer que a la hora de abordar esta regulación hay dificultades no es una tarea simple

es un trabajo complicado estamos hablando de un aspecto muy técnico que tiene vicisitudes muy concretas y que además

desborda las fronteras de los estados por lo tanto nosotros reconocemos aquí que esto es algo difícil pero

también lo tenemos que advertir que estamos atentos a cómo se produce esa regulación que nos hallamos expectantes ante cómo

pueda afectar a nuestro país pueda afectar a nuestra cultura pueda afectar a nuestra lengua y tenemos que decirlo también no solo estamos atentos no solo estamos expectantes

sí que es cierto que lo que hemos visto hasta ahora por lo que hemos podido conocer de ese anteproyecto pues no nos ha gustado demasiado y sí que queríamos llamar la atención especialmente sobre dos cuestiones

por un lado el texto que hemos conocido no respeta el ámbito competencial de euskadi el ordenamiento jurídico del que disponemos establece que

esto no se cumple en este texto debe quedar un margen para que euskadi pueda desarrollar el ámbito que le corresponde y como hemos dicho esto no se cumple y esta invasión competencial que nosotros queremos poner de manifiesto hoy aquí

y por eso nosotros hemos querido incluirla en el debate a través de nuestra enmienda

un asunto muy importante para nuestro grupo si el parlamento vasco va a hacer un pronunciamiento

que pongamos de manifiesto que se está vulnerando el marco competencial y que intentemos hacer de salvaguarda para que esto no se produzca eta beste alde batetik

egin beharra dago y si somos sinceros y yo creo que debemos ser sinceros nadie duda realmente de que cuando llegue el momento

si los derechos lingüísticos y culturales de este país de euskadi no son respetados nosotros vamos a ser muy contundentes como lo hemos sido

que haga falta lo va a ser el grupo euzko abertzaleak en este parlamento lo va a ser como lo viene siendo el gobierno vasco que ya ha presentado un informe de alegaciones

todas estas cuestiones que estamos comentando hoy aquí y tratando que ese texto sea mejorado

el grupo vasco en madrid a la hora de negociar el texto de la ley

los demás grupos mire somos el pnv y la defensa de este país

y nada debería hacer pensar que vaya a ser ahora de otra forma pero por si alguien tuviera alguna duda voy a aprovechar para recordarlo se lo recuerdo

a los demás grupos si nuestros derechos lingüísticos culturales nuestro marco competencial están atacados están en riesgo nosotros vamos a ser una garantía para su defensa

que como todos saben lo está también está ser gente seria

que sabe cuándo es el momento de actuar y cuándo hay que esperar y en ello estamos con prudencia porque como hemos dicho

estamos hablando de un anteproyecto que pasará por el consejo de ministros

que tendrá que debatirse por los grupos por lo tanto quedan muchas etapas y no vamos a precipitarnos ahora además

existen declaraciones del ministro iceta en la línea que

hablando de que se va a respetar el marco competencial y de que las lenguas oficiales del estado van a tener su lugar por lo tanto nosotros consideramos

instar a mejorar en aquello que viene que quejarnos por los errores que se hayan podido cometer que es mejor negociar y colaborar para aprobar un texto mejor que confrontar

eso sí si en un momento dado hay que denunciar denunciaremos

y si debemos confrontar confrontaremos pero como se suele decir cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente y todavía no hemos llegado a ese río

en la doctrina constitucional española que se llama

en la que se trata de un diálogo ficticio entre un jurista persa y un jurista español y el jurista español está intentando explicarle al jurista persa

y la verdad es que el debate que estamos teniendo hoy es un debate también un poco particular porque

sobre una cuestión que se está tratando que todavía no se está tratando en el congreso de los diputados que efectivamente el gobierno de españa el gobierno de la nación ha preparado un anteproyecto de ley que está siendo informado por distintas instituciones ahora

plantea una serie de cuestiones pero digo que es complicado porque claro tenemos que es un anteproyecto de ley pero que todavía no está del todo registrado en el congreso

hay una serie de grupos que por lo visto son bastante influyentes en el gobierno español o eso parece y

del proyecto de ley además parece que casi hay un acuerdo global para que esa influencia se materialice con lo cual digo que es un debate complicado digo esto porque muchas veces les he traído yo alguna propuesta que efectivamente podía tocar un tema de impuestos una competencia nacional y se me

metafóricamente hablando con la cuestión de que si es una cuestión

respeto la propuesta que han presentado y que han acordado finalmente los grupos una pena porque nosotros íbamos a apoyar íbamos a votar favorablemente a la del gobierno a la de los grupos que sostienen al gobierno

no la apoyaremos en estos términos vamos a ver se nos ha presentado inicialmente una propuesta en la que se hablaba

digamos traslación de lo que es una directiva europea que por cierto

la primera cuestión preocupante tanto la propuesta inicial

como las enmiendas a la totalidad como la enmienda que finalmente se ha acordado hablan todo el tiempo de la directiva

dos mil dieciocho barra ciento ochenta esa directiva no existe entiendo que se están refiriendo a la directiva de la unión europea

que no ciento ochenta digo para que los servicios jurídicos de la cámara tomen nota

que es la que se va a aprobar finalmente que es una directiva que lo que hace es modificar otra directiva anterior

para los estados miembros les voy a hacer señorías con su permiso unas pequeñas reflexiones

una transacción que va a salir adelante pero sí me gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre esta cuestión lo cierto es que la directiva esta a pesar de lo que se ha dicho en alguno de los turnos de intervención

no es una mera transposición de una serie de normas

sino que el gobierno ha aprovechado para presentar todo un proyecto de ley nuevo totalmente nuevo que va a sustituir a la vigente ley

que inicialmente la propuesta criticaba por ser conservadora mercantilista y tal echo de menos la palabra neoliberal pero bueno entiendo que ha sido otra errata pero entiendo que es otra errata esto para la siguiente seguro que lo pueden corregir

no es tan autónomo respecto a los poderes económicos y políticos como en otros lugares en euskadi son autónomos o no son autónomos una pregunta también de cierto interés

digo por repasar un poco el procedimiento cuando se presenta una directiva que pueda afectar a la distribución interna competencial de los estados

no le gustaba lo que establece la directiva porque en la tesis del grupo proponente es que hay una mera transposición de unas cuestiones

su proyecto el texto en el proyecto de ley hay un proceso que se aprobó en una de las últimas reformas de los tratados de la unión

cada vez que la mesa nos envía los acuerdos de la cámara suele incluir al final una breve mención

ya que ha criticado tanto esta cuestión no hiciera unas consideraciones

de las normas europeas dicen comunitarias pero la mesa debería corregirlo porque ya no es comunitaria deberían ser europeas

en cuanto al proyecto el anteproyecto de ley que

hombre pues sí que reconocía digo yo la preocupación principal que era dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de españa el artículo cincuenta si mal no recuerdo de ese anteproyecto se mencionaba la diversidad cultural

otra cuestión que aquí se plantea es que parece que es que

oiga es que la legislación actual ya incluye cargas importantes de destinar una parte importante de los beneficios superiores

para la elaboración y para la participación en producciones de cine de cine español oiga y también dentro de esto un porcentaje importante

en cualquiera de las lenguas cooficiales de españa ya estaba establecido el matiz cuál es entiendo que el matiz es que dentro de las lenguas cooficiales ustedes lo que quieren es que obligatoriamente sea en euskera o sea no que sea en cualquiera sino que obligatoriamente sea en euskera

que si sale adelante en el congreso si esta mayoría se repite en el congreso será una carga más adicional para estas empresas

este tipo de cuestiones no se crean ustedes que pasan inadvertidas es decir al final

esa es la razón de ser de obligar a establecer un porcentaje mínimo aunque no haya demanda

a hacer es que se produzca una digamos una repercusión del gasto

en cuanto a las consideraciones de fondo la crítica fundamental que yo

al proyecto o a la propuesta original era sobre todo el tema del modelo para promocionar

la cultura etcétera las mayoritarias minoritarias etcétera las mayoritarias parece que no hace falta promocionarlas aunque estaría bien definir lo que se entiende por cultura

hay dos opciones esto hasta aquí yo creo que podemos coincidir todos

todas las administraciones de euskadi o como dice el grupo proponente que no le gusta tampoco la palabra euskadi

sí que incentiva producciones en euskera pero vamos y con mucho dinero de todos nosotros esa parte siempre se ejecuta señorías y ya me oyen hablar de que aquí siempre le critico al gobierno que no se ejecuta gran parte del presupuesto

por lo tanto ya hay una política en este caso de incentivos establecer la política obligatoria es decir establecer el tema de los porcentajes que hasta cierto punto ya se ha hecho pues puede chocar no solamente con normativas en este caso sí de libre mercado sino sobre todo porque puede imponer ciertas

limitaciones y ciertas condiciones a operadores privados una cosa es que se haga con el sector público porque claro el sector público entiendo que no les preocupa ya lo tienen suficientemente controlado

sino que también quiere ser el sector privado y ahí es donde va a haber un problema porque si saliera adelante

con un texto que establezca efectivamente tal nivel de concreción es bastante probable de que esto acabe en la justicia europea bastante probable de que acabe en la justicia europea y que se considere

a sacar la bola de cristal como me dice alguna vez

pero no sería descartable que se recurriera por eso yo creo que la regulación inicial como estaba en materia de promoción de lenguas era

bastante razonable e intentaba compaginar un modelo de incentivos con un modelo de obligaciones que no fueran desproporcionadas

y por eso me parecía que era bastante razonable y por eso también el texto

de entre los dos grupos que sostienen al gobierno me pareció un texto razonable

parlamento vasco insta al conjunto de instituciones competentes a que se respete el ámbito competencial de euskadi por supuesto que la trasposición de la directiva

porque además es el texto que se repite tanto en la directiva mil ochocientos ocho como en el anteproyecto todavía de la ley general audiovisual esa es la explicación de la esa será la razón por la cual finalmente nosotros votaremos en contra

izan ez den bezala siento señor alonso haberle abrumado

no era mi intención desde luego no era de ninguna de las maneras mi intención lo único procuro ir de cara y como le decía antes a la compañera uruguaya

creo que el acuerdo que hemos conseguido hoy es un bonito claro pero esta ley pues tiene bastantes lados oscuros pero como bien decía

está en proceso y precisamente por eso valoramos tanto este acuerdo porque creemos que este es el momento también de que el parlamento vasco marque una posición al respecto horregatik

y si decía que es momento para manifestar la alegría

o la satisfacción por lo menos por el acuerdo que hemos alcanzado el amplio

quiero decir que hoy estoy doblemente alegre primero por el buen acuerdo que hemos alcanzado y segundo porque

que habíamos presentado la enmienda inicial que habíamos presentado y bueno

en esta actitud que él tiene casi de profesor de ponernos nota a los demás

nos va a dar casi un aprobado nos ha puesto pegas pero nos va a dar un aprobado también ha hecho referencia

a que le gustaba nuestro texto pero que no le gusta el texto actual si usted hubiera presentado una enmienda a lo mejor hubiera podido participar de la negociación pero

pero sí que quiero decir que nosotros estamos satisfechos y estamos contentos con el acuerdo que hemos alcanzado y de hecho consideramos que es bastante más natural

brevemente no iba a intervenir pero hombre ya que el señor díez me ha interpelado no le voy a hacer el feo

vamos a ver la enmienda que ustedes presentaron era una enmienda que yo creo que era razonable por eso me pareció lo lógico votar a favor a diferencia de lo que hacen los grupos del gobierno que siempre están intentando desactivar las iniciativas que hace la oposición yo cuando veo una iniciativa que está bien pues en lugar de hacer una enmienda artificial planteó votar a favor y precisamente es lo que iba a hacer

hacer una cosa distinta y bueno pues hoy habrán ganado aquí una votación

pero ya les digo yo que creo en mi humilde opinión yo no soy quién para dar lecciones a nadie

que la forma con la que se busca o con la que se pretende el fomento

de un idioma en este caso el euskera no es la adecuada del sistema que se está proponiendo el sistema actual que insisto realiza un equilibrio entre lo que es

un pequeño porcentaje con un cierto amplio de maniobra para poder dedicarlo a ciertas cuestiones es decir entre

un sistema bastante razonable que en su día por cierto a su grupo también le pareció bastante bien yo por eso

y destacar otra cuestión y es que desde un punto de vista también general de lo que es la promoción de los dos idiomas y etcétera

el problema está cuando ya las instituciones públicas que también son reguladores no solamente son agentes sino que también son reguladores que son dos cosas distintas

yo creo que es muy importante que los operadores privados cuenten con un margen de maniobra porque ellos están destinando unos capitales unos dineros unas inversiones

hay unos trabajadores y la sociedad entera se ve beneficiada por eso si queremos incentivar ciertas cosas pues oiga ya se está haciendo a través de muchísimo dinero y muchísimos millónes de euros por cierto del presupuesto nuestro y de los presupuestos de otras instituciones en lugar de eso lo que se intenta hacer es controlar el sector privado

que no lleva a ninguna parte y que va a ser en todo caso contraproducente para el objetivo que se pretendía buscar muchas gracias señorías eskerrik asko gordillo jauna

muchas gracias señora presidenta

se presenta señorías ante ustedes hoy una proposición no de ley una iniciativa que lo que pretende

a que cree en el seno del departamento de seguridad concretamente en lo que es la ertzaintza

una unidad específica que luche o que esté especializada en la lucha contra las bandas juveniles y organizadas pedimos además en nuestra iniciativa que se

y pedimos también que el señor consejero y vicepresidente primero

de la implementación de estas medidas en primer lugar una cuestión

con una noticia que pensábamos que no iba a suceder nunca por estos lares la veíamos por la tele a veces casi ojipláticos y ayer vimos que este tipo de cuestiones

de que una persona en un momento determinado agreda con armas etcétera de manera indiscriminada a un colectivo igual que no estamos libres de todo tipo de violencias

que está ahí siempre sobre la mesa el tema de la seguridad es un tema esencial la razón de ser del estado del poder público

de sus derechos sociales particulares etcétera yo sí quiero manifestar una preocupación y es que en términos generales lo cierto es que cada vez más y sobre todo

está más presente en las noticias por temas de seguridad es un tema que realmente nos preocupa a nuestro grupo

es una preocupación entiendo que debe ser compartida por el gobierno por tanto desde aquí el apoyo de nuestro grupo el mío personalmente por supuesto

que hizo ayer y su trabajo en general a pesar de los medios con los que a veces no cuenta y sobre todo también el apoyo al gobierno para que desarrolle todo tipo de iniciativas que contribuyan a que tengamos dentro del marco estatutario constitucional una policía moderna y adaptada a las necesidades de la sociedad bien cuál es la situación que tenemos nosotros en la ertzaintza señorías que seguro que ustedes la conocen mejor que yo

que digamos que carece de unidades especializadas

históricamente en euskadi sí que había un cierto desarrollo una cierta especialización es lógico

lo que pasa es que después parece que se intentó alterar o cambiar ese modelo de policía se adoptó ese concepto de policía de proximidad

que tanto se decía en esos planes que nos presentaba el departamento de seguridad

el resultado fue que desapareció fundamentalmente la especialidad por unidades

básicamente basada como ustedes saben en comisarías prescindiendo como digo de unidades especializadas y el modelo británico que es en el que se basa también este

en el caso del reino unido en inglaterra en concreto pues ya han tenido ha habido momentos en los que han tenido que asumir o que enfrentarse a grandes movilizaciones de personas contener etcétera y se han demostrado ahí las carencias y lo han ido corrigiendo poco a poco por eso yo creo es una buena oportunidad esta para la reflexión conjunta y para que el gobierno adopte la decisión de tener una unidad especializada sabían ustedes señorías que la ertzaintza no tiene una unidad antidroga una unidad especializada como

si el tema de la lucha contra los estupefacientes está en el plan estratégico del departamento

puede decir el señor consejero si debatiera con nosotros que sería extraordinario

en comisarías etcétera tal y hombre en cada comisaría pues efectivamente tal

especializada en este sentido carecemos carecemos de una unidad también en el ámbito de la persecución en este caso de delitos

y que son bandas juveniles que están organizadas que son violentas y que por tanto sí hay que reaccionar por la vía policial en este caso por eso nosotros creemos que es necesario tomar cartas en el asunto y especializarnos las otras policías

tanto los nacionales los federales como los federados en algún caso

hay profesionales muy especializados y en eso es en lo que se está sosteniendo ahora mismo yo diría que casi con alfileres en algunos casos toda la estructura eh porque tenemos unos profesionales que son buenos

y lo están dando todo pero lo cierto es que no tienen en este caso

que a nuestro juicio sería necesaria y que es una estructura digo que la tienen todas oiga es que el tema de la delincuencia juvenil organizada pues en la policía nacional por ejemplo lo lleva la brigada de inteligencia

es una situación donde además puede haber y así lo demuestran las estadísticas no me invento nada hay un componente también de extranjería importante

la cuestión que yo me planteo es por qué no hacemos lo mismo con la policía autónoma con la nuestra con la ertzaintza por qué no dotamos a nuestra policía

de una unidad en este caso especializada

que sea una unidad específica que se dedique a esto insisto el contraargumento esencialmente aquí puede ser oiga sí que hay personas especializadas en esta cuestión ya pero está por comisarías

y entonces aquí al final se realizan labores muchas veces en este caso de monitorización y entre las carencias que tenemos que tenemos mil ertzainas menos de los que tendríamos que tener en este momento trabajando el señor consejero lo sabe son datos

creo que el último recuento eran siete mil cuarenta y uno él tendrá mejores datos que yo

con una serie de cuestiones que debatiremos en esta cámara quizá en otro momento pero hombre yo creo que sí que es necesario si queremos dar un servicio a la ciudadanía

esta es la propuesta para terminar señorías solamente quiero recordar la importancia de tener una buena policía

y que esté en coordinación con el resto de policías que trabajan también en euskadi porque lo cierto es que al final muchas veces por las carencias es que

dadas las carencias que muchas veces tiene la ertzaintza al final los que tienen que

en el país vasco lo cual a mí me parece estupendo me parece estupendo pero oiga

una colaboración importante entre esos tres grupos fundamentales y también las policías locales por eso señorías les pido hoy en este último punto del orden del día

presentada por el grupo vasco popular ciudadanos de dotar a nuestra

que se nos han presentado las enmiendas a la totalidad bueno en este caso

la de los grupos que sustentan al gobierno a diferencia del caso anterior aquí no me ha gustado no me ha gustado es decir

que no tiene estructuras eficaces y eficientes por tanto supongo que será la propuesta que saldrá finalmente adelante

hay muchísimo margen muchísimo margen de mejora y muchísimo margen de maniobra y aquí es una lástima señor consejero pues aquí nos tendría a su lado para realmente

en cuanto a la propuesta la enmienda a la totalidad del grupo elkarrekin podemos

la misión de las enmiendas a la totalidad está bien en realidad lo que se pide es la realización

instar a que se realice un estudio diagnóstico multidisciplinar

protagonizada por personas jóvenes en el país vasco y a presentar sus conclusiones en esta cámara junto con mecanismos etcétera dicho diálogo

me parece muy bien que se haga este estudio pero no es el objeto del debate

a ningún grupo no estoy digo porque es lo que se deduce

que estoy intentando criminalizar algún sector en absoluto pero si es que yo no tiene usted más que leer la prensa hombre será la prensa que como decía antes la iniciativa está controlada por los poderes fácticos pero será la prensa la que lo dice porque claro es la prensa la que lo dice y

es un tema que la verdad yo cada vez que hoy por la calle y me paran pues estas cuestiones siempre salen

no solo no tengo ningún inconveniente sino que señor martínez zatón si presenta usted esta iniciativa

que puede tener y que puede ser muy valioso para el trabajo y la planificación sobre todo de lo que puede ser la seguridad en un verdadero plan estratégico pero no tiene que ver con la propuesta que hoy se presentaba en este caso

me parece bien la propuesta que usted hace pero sinceramente creo que no tiene que ver con lo que estamos proponiendo hoy en día porque si hay un tema realmente de seguridad es que lo estamos viendo pues yo creo que eso hay que acometerlo

que está en todas las policías es que todas las policías están teniendo

enfrentándose a este tipo de problemas y por tanto todas las policías están creando unidades especializadas y ese es el sentido de la propuesta

arratsalde on señor gordillo ha adivinado por dónde

primer punto para usted el problema no es el texto de su iniciativa usted tiene un problema ya que el partido popular ciudadanos ante un suceso

en amorebieta un terrible suceso que ha dejado a un chaval en lo cita usted en la exposición de motivos y que gracias además a la colaboración entre la policía municipal de barakaldo y la ertzaintza pues se ha detenido a una serie de personas y eso está siguiendo su cauce ustedes

de suceso trajeron una iniciativa hablando de bandas juveniles poniendo un foco en un problema que luego los datos

que al menos nosotros tenemos es totalmente minoritaria no décimos que no haya que tratarlo

si usted a golpe de suceso intenta sí criminalizar en general a un sector de la población

labor como grupo parlamentario pues es intentar dimensionar el problema sabiendo que puede existir saber cuál es la dimensión de ese problema para saber si las medidas que la ertzaintza el departamento de seguridad tiene en vigor en este momento son suficientes

medidas policiales pero claro usted se muestra muy preocupado por esta situación hace una propuesta pero lo que le dice al gobierno que ante un problema de esa dimensión que usted habla le dice que el gobierno vasco traiga una propuesta mágica en tres meses aquí y la presente el señor consejero y

como si esto se pudiera hacer deprisa y corriendo seguramente

euskadi ahí se dan una serie de

dice que esto solo representa el cinco por ciento del total de las acciones protagonizadas por menores y cuando habla de pandillas

no llega al uno por ciento ese es el problema que hay nadie lo está negando pero esa es la dimensión del problema que está habiendo y se produce además en unos momentos muy concretos de la semana

y de la noche entonces precisamente porque su iniciativa es una iniciativa presentada a golpe de titular usted lo ha dicho está en la prensa

hacer propuestas serias y hacer propuestas que se puedan debatir con calma y con serenidad en este parlamento en el mismo plan de seguridad ya dice que hay

nosotros no tenemos los argumentos suficientes ahora mismo para decir si es suficiente o no es suficiente

en este tema de la violencia protagonizada por bandas juveniles

personas ya mayores de edad se habla de elaborar un diagnóstico nuestra propuesta ha ido más allá de ahí por qué porque ese diagnóstico según ese plan de seguridad lo va a hacer la ertzaintza únicamente

no puede ser solo una solución policial por eso lo que estamos diciendo que ese diagnóstico

locales tiene que colaborar justicia tiene que colaborar administración

la juventud tenemos un consejo vasco de la juventud que estoy seguro que estaría dispuesto

otros grupos también ese diagnóstico al que nosotros no le hemos puesto fecha y que sabemos que no va a salir

nos gustaría si no es hoy que se pudiera hacer para saber todo el mundo la dimensión real que pueda tener este problema pues lo que nos tiene que decir es

o si hay que tomar otras medidas y desde elkarrekin podemos izquierda unida lo tenemos claro lo he dicho ahora la solución no puede ser solo policial si

superior a la que los datos por lo menos que tenemos nosotros indican y si no que tiene que ser social y también institucional y además hay otros mecanismos que usted

de los elementos de esa unidad podría haber citado

como son el diálogo y como son la mediación también con los grupos juveniles soluciones a largo plazo por tanto y sí ha acertado como le decía

que iba a ir por la de la juventud que es lo que ustedes están haciendo pleno a pleno en esta cámara

dos iniciativas para abordar dos problemáticas que son en todo caso minoritarias en la población joven el tema de los botellones y el tema de la violencia

jóvenes mejor dicho creo que podría ser el término creo que el partido popular y ciudadanos se lo tiene que hacer mirar

joven no han presentado ni una sola iniciativa contra la precariedad juvenil

a cientos y miles de trabajadores y trabajadoras especialmente jóvenes no van a respaldar el programa de garantía juvenil que está inserto en los presupuestos generales del estado las enmiendas que han presentado a la ley de juventud van en el sentido de recortar

el sentido contrario a las enmiendas de elkarrekin podemos izquierda unida que avanzamos en derechos para la gente joven

donde viven mayoritariamente las personas jóvenes porque para ustedes como ha dicho el señor casado cualquier persona con nómina puede alquilar un piso creo que les toca un poco más de calle y hablar con las personas jóvenes también están en contra de la subida del salario mínimo interprofesional a novecientos cincuenta euros cosa que beneficia

mayoritariamente a los primeros empleos por tanto

o el escaso interés que tiene el partido popular ciudadanos de presentar iniciativas para mejorar

nuestra iniciativa ha ido para enmendar a la totalidad la suya para tratar este tema con la suficiente seriedad con el suficiente tiempo con el suficiente buen tino porque estos temas no se pueden trabajar a la ligera y por eso pedimos aunque sabemos que hoy no va a salir adelante

realmente de una forma pues científica si puede ser los datos concretos que pueda tener este fenómeno de la violencia protagonizada por personas jóvenes esto no se puede hacer como le digo a golpe de titular sino se tiene que hacer con seriedad con calma y con grandes consensos para no caer en errores que creo que su iniciativa el tono de su iniciativa

el espíritu inicial de su iniciativa no van por el buen camino eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

presidenta señorías yo he intentado

en su exposición aquí qué diferencias podía haber con el texto que nos había presentado con la introducción que nos había presentado a la

y lo único diferente que he escuchado es que no hay estructuras eficaces y eficientes hoy en la

luchar contra el segmento de delincuencia que usted ha expresado aquí en realidad lo que nos trae aquí

en la exposición de motivos y razonablemente si arranca allí y hoy nos plantea que tiene que haber un cambio de modelo organizativo en la ertzaintza para perseguir los delitos

de cómo aquel suceso u otros sucesos alrededor de aquel no se han saldado con una intervención

es decir si hubiese quedado aquel delito sin investigar si no se hubiera detenido a las pocas horas prácticamente a todos los autores

un suceso con unas consecuencias que derivan en un fracaso policial pero esta no es la realidad y por lo tanto cuando usted nos plantea aquí

lo hace en comparación con otros modelos pero no lo hace en comparación con otros modelos porque haya otros modelos que sean más eficaces que este sino bueno pues porque esos otros modelos darán la eficacia que den pero

a la persecución del delito y al resultado de esa persecución es evidente que si el actual modelo organizativo de la policía autónoma

detener a prácticamente todos los intervinientes de ese suceso que le inspira a usted aquí es evidente que dentro de la organización policial hay una estructura potente importante una estructura que hace un seguimiento y un diagnóstico exhaustivo de lo que sucede y que tiene bastante motorizado

esas personas que más o menos se mueven en torno a este tipo de delitos por lo tanto está bien que cualquiera

de un modelo de organización policial diferente pero hombre es bastante sensato hacerlo a raíz

no da buenos resultados no es exitoso de hecho fíjese hasta quienes lo plantean desde otros ángulos de la sociedad porque también

siempre recalcan y ponen por delante que la policía autónoma está perfectamente preparada para atender y para responder ante este tipo de delitos

puede ser un debate siempre el modelo de organización policial pero

cuando no resulta cuando fracasa cuando no produce seguridad para la ciudadanía no es el caso por lo tanto aquí estamos ante un modelo policial que es

en el que la policía autónoma en vez de dividirse en compartimentos en función

más generalista pero no por ello con menos eficacia y con menos eficiencia en la investigación y en los resultados

de seguridad para el país vasco ahí verá que hay una serie de líneas de actuación que abarca absolutamente todo no solamente abarca el seguimiento del análisis sino que abarca la prevención abarca

del modelo educativo el comportamiento de la educación familiar cuál tiene que ser el modelo o el nivel de coordinación con la fiscalía

entre las policías que claro que se hace y precisamente porque se hace todo eso es por lo que nuestra enmienda no puede ser de otra forma que continuista porque lo que usted propone cuestiona el modelo y lo que nosotros décimos es que el modelo está funcionando y entonces

en los medios y siempre es bueno profundizar en las coordinaciones y con ello tener buenos resultados y por eso hombre no partimos de cero no

luego no podemos hacer otro planteamiento diferente que el que estamos haciendo que es un planteamiento continuista ciertamente el modelo de seguridad siempre puede ser discutible de hecho quien sufre la delincuencia y quien tiene un daño como consecuencia de la delincuencia probablemente ningún debate ni ninguna propuesta ni ningún planteamiento le producirá o le resarcirá de su daño o de su dolor el problema está en saber si nosotros desde este servicio público que significa la seguridad producimos la suficiente seguridad en general para la ciudadanía y yo creo que es así es así por la valoración que tiene que tiene una valoración porque nadie cuestiona que nuestra policía sea una policía que dé seguridad y que sea eficaz y por lo tanto no hay ninguna razón para un cambio de modelo de organización

siempre está en discusión cuáles son los medios porque también se habla de los medios

en otras ocasiones al calor de otros sucesos y se han ido haciendo planteamientos en un sentido y en otro si los

este es un debate que está siempre abierto pero lo sustantivo de este debate es si este debate obedece o no a un fracaso y no obedece a ningún fracaso todo lo contrario y yo creo que sería bueno para evitar y despejar dudas

que tras el suceso de amorebieta que produjo esta

el resultado de la actuación policial ha sido el resultado de éxito gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

euskal herritarren oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak bermatzeko en primer lugar nuestra enmienda parte de una realidad que no es otra que la existencia dentro de la ertzaintza de medios protocolos estrategias y formación

en los que hay que seguir trabajando y profundizando cómo no en esa mejora del día a día y en ese

en este sentido instamos a que el gobierno vasco prosiga con las distintas iniciativas llevadas a cabo hasta la fecha

sortzea que no se cree una unidad específica señor gordillo no quiere decir que no se tenga en cuenta

y además tenemos que tener muy presente que el departamento de seguridad tiene ya un camino recorrido y una propuesta que ya hizo en este parlamento la comisión correspondiente al presentar el plan de seguridad al que ya se ha aludido desde el año dos mil dieciocho tenemos que tener en cuenta que está trabajando dentro de la ertzaintza un equipo estable de personas menores que a efectos prácticos vendrían a constituir prácticamente la unidad de menores de la ertzaintza por qué hago esta referencia porque no podemos olvidar que en muchos casos quienes pueden formar parte de esas bandas

son menores de edad por lo tanto esta vertiente debe ser tenida en cuenta en el caso de los

que de los quince partícipes ocho eran menores fue esta una actuación que en opinión de nuestro grupo fue

eficiente hay por lo tanto un camino recorrido

prácticamente no ha hecho referencia a la parte justificativa de su proposición no de ley en la que venía a decir que ni se ha hecho nada ni se hace nada

menores que cometen delitos y menores víctimas de delitos

no partimos de cero pero es cierto que hay que seguir como decía desarrollando acciones en orden a evitar

una serie de datos que son conocidos están contenidos en el plan de seguridad dos mil veinte dos mil veinticinco de lo que supone en realidad de lo que implica en realidad cuantitativamente este

no obstante si ustedes repasan en el contenido del plan de seguridad pública de euskadi verán que se contemplan distintas líneas de trabajo

el plan de acción contra los nuevos grupos juveniles organizados y violentos es decir

creo recordar que usted estuvo presente hay un apartado concretamente ligado a los

que precisamente contempla esta cuestión con unos objetivos muy claros identificar detectar a esos nuevos grupos y elaborar un diagnóstico difundir a toda la ertzaintza la información relativa a ese fenómeno delictivo sensibilizar en el ámbito educativo y familiar el señor martínez

informar en el ámbito judicial concienciar en el ámbito social comunicar en el ámbito institucional y en definitiva garantizar la seguridad pública

y la posible alarma social que pueda generar este tipo de hechos como ven hay recorrido hay un recorrido y hay una planificación se es consciente del problema y también de cuál es su dimensión y se han diseñado ya estrategias para atajarlo en la medida de lo posible por lo tanto

herramientas específicas para prevenir actuar detectar e investigar en todo tipo de violencia en este caso que pueda ser cometido por menores o jóvenes y no menores en definitiva

ofreciendo una respuesta integral a la misma desde todos los servicios

la estructura de la ertzaintza azken batean ertzaintzak

que los instrumentos implementados por la ertzaintza están demostrando en nuestra opinión músculo preventivo

de los autores de delitos graves ante lo cual

vamos a mantener el voto afirmativo para nuestra enmienda y votaremos negativamente a la proposición no de ley que se nos hace desde el grupo partido popular ciudadanos animar

conlleva una victimización primaria digamos a sus víctimas directas de nuevo todo nuestro afecto y solidaridad a todas ellas y una secundaria

percepción de seguridad y parece que esto se puede resolver de una forma sencilla con una unidad policial dice el proponente que

especializada parte de la fiscalía o de órganos judiciales no he encontrado semejante solicitud sí alguna valoración o alguna

solicitarían esta unidad especializada y efectivamente además de en un hecho concreto sucedido en zornotza amorebieta también ha sido un sindicato

y que efectivamente solicitan una unidad de estas características y lo pongo en contexto porque es en un momento de elecciones sindicales y un momento en el que quieren además enfrentarse a esas elecciones

eta are gehiago esango nuke el señor gordillo nos dice que casi cualquier policía a lo largo y ancho del mundo que se precie

he estado mirando otras experiencias de otros cuerpos policiales y no he encontrado una unidad específica

en el estado se contabilizan entorno son unos datos de hace cinco años en torno a cuatrocientos cincuenta bandas organizadas y

pues bien la policía nacional seguro que es referencia de policía para el proponente tiene dieciséis unidades de lo más diverso geo tedax brigada de investigación tecnológica unidad de caballería canina unidad como la que usted propone dice no lo llevan desde inteligencia

que me diga que al menos la guardia civil un montón de unidades seguridad ciudadana tráfico montaña servicio seprona

hay especializaciones de investigación especializaciones en varios ámbitos no tienen una unidad pero es que ni en francia que tienen unos problemas más graves de toda europa tienen

es más han decidido que no se puede enfrentar esto desde una unidad específica sino que tiene que ser el conjunto del colectivo policial el que sepa el que esté formado el que conozca cómo enfrentarse a estos hechos o en el reino unido la british national police no tiene una unidad de este

y le vuelvo a decir dígame un solo modelo de estructura policial con una unidad de este

las razones que alegan los grupos son distintas variopintas no por empezar por el orden que han intervenido la del señor

de verdad usted presenta la iniciativa que ha presentado aquí como enmienda a la totalidad como una iniciativa autónoma yo se la apoyaré porque creo que es bueno y es necesario efectivamente que se realicen este tipo de estudios la aprobaré pero creo que también la propuesta que traía yo aquí la parte dispositiva ahora si no le gusta la justificación pero la parte dispositiva yo creo que era bastante necesaria

me ha creo que nos ha acusado al grupo de criminalizar y tal y no sé qué a la juventud oiga la juventud

pero nosotros criminalizar a un sector de manera preventiva en absoluto que por cierto parte de la argumentación que ha utiliza otro portavoz y a la que ahora me referiré

me parece que ya hemos corrido cuando se quiere se corre mucho y yo creo que esto es una cuestión en la que habría que tener una cierta celeridad por eso hombre que no le parezca seria mi propuesta le puede gustar o no pero

que las policías modernas actualmente aunque la unidad no se llame de delincuencia juvenil específicamente sino que lo lleve un grupo dentro de inteligencia

es una policía que puede ser un buen modelo para intentar copiar o imitar las cosas que funcionen bien

se llame como se llame que normalmente las policías europeas

dentro de lo que son las unidades de inteligencia el señor consejero lo sabe bien por la complejidad que esto tiene todos los grupos han reconocido la complejidad del problema y la gravedad del problema

pues mire yo creo que la propuesta que se presentaba no estaba mal no la he hecho yo solo también la ha hecho algún sindicato mayoritario de la ertzaintza es decir ya no soy yo no nuestro grupo

es la propia policía ya la que parece que está cuestionando el modelo a mí sí me parece importante porque luego el señor martínez zatón pues hombre si me permiten la licencia con toda fraternidad pues hombre

habla del plan juvenil y tal no era eso le vuelvo a insistir presente esa iniciativa yo se la apoyaré pero no era eso el debate el señor

una excelente defensa de su posición lo que pasa que la argumentación

lo que tenemos que hacer es equiparla para que estas cosas no pasen por eso normalmente este tipo de unidades se suelen incardinar

reconozca usted que funciona se comete un delito y la policía reacciona bien claro por supuesto

por cierto una cosa es la policía otra el gobierno o la dirección de la policía son cosas distintas yo a la policía por supuesto que se lo reconozco y a la ertzaintza faltaría más trabajo extraordinario y máxime con los medios que tienen

la cuestión es que lo que hay que hacer precisamente es prevenir y oiga no sé parece ser que nuestro grupo es el único que ve estas cuestiones que es un tema que hay que atajar

precisamente para evitar que las cosas sucedan para evitar que las cosas sucedan hombre cuando ya suceden por supuesto claro cuando suceden claro llega la policía

de manera preventiva puedan evitarlo me parece que esa es la función que tenemos aquí como parlamento yo por eso señorías

pero bueno eso es otra cuestión yo la verdad que ahí

sí que me gustaría que reflexionaran todos ustedes o que reflexionáramos señorías sobre la cuestión tenemos una organización policial desde lo que es la estructura que es distinta de las demás

a lo mejor somos los únicos que estamos en lo cierto y el resto de policías están equivocadas la única precisamente que tiene este tipo de organización y hombre

yo creo que se le podría dar una vuelta y por eso hemos hecho esta propuesta que

una situación determinada y acabo enseguida pero hombre es que yo

con un problema de estos y la verdad es que el tema de la seguridad me está preocupando de manera creciente y no será la última iniciativa que traigamos a esta cámara sobre cuestiones de seguridad muchas gracias

el programa de su iniciativa que también tenemos problemas con el contenido también es un

del momento del motivo ustedes presentaron una iniciativa para

que todo el mundo aquí fuera lógicamente rechaza apoyamos la labor policial de la policía municipal de barakaldo de la ertzaintza de la justicia

de acuerdo y traen una iniciativa para poner el foco en un problema que

terminamos de consensuar todos los métodos pero

también usted se ve obligado a bajar a la tribuna y bajar el tono y generar

otro tipo de debate pero la respuesta por nuestra parte es exactamente la misma no estamos de acuerdo con lo que ustedes están

ese fenómeno complejo de las bandas violentas organizadas que los menores además de que

una parte muy minoritaria puedan ser protagonistas de algunos delitos principalmente como se ha dicho creo que ha sido el señor atutxa también son víctimas de esos delitos y es un problema que preocupa

de la sociedad pero creo que se tienen que gestionar con medios policiales sí por supuesto pero con medios más multidisciplinares por eso nosotros proponíamos que ese estudio que

introducido en el plan de seguridad pública

policiales porque sabemos que no puede ser una respuesta solo policial a un fenómeno tan

y afortunadamente vivimos en una sociedad muy segura pero tenemos un problema y creo que también se ha dicho en la tribuna que la percepción que tiene la ciudadanía sobre su propia es mayor de la inseguridad real que existe en las calles y creo que desde los poderes públicos hay que ser responsable ante esa situación no negar la realidad de lo que está sucediendo pero tampoco amplificarla y sobre todo no utilizar el populismo

ampliar un foco y esto lo digo por ejemplo el ayuntamiento de bilbao encarga una serie de encuestas a unas encuestadoras para reflejar lo que es la realidad

de bilbao a mí me llamaron hace no tantos meses pero esto lo conocíamos también de legislaturas anteriores el número de preguntas

de seguridad llevan a que se fomente esa sensación de inseguridad ante casos concretos que pasan

todos y todas y no voy a hacer ahora de escudero del gobierno pero el tema de prisiones no confunda la prisa que se ha tenido y que nosotros

lo criticamos con la creación de aukerak con el debate que ha habido durante estos años en esta cámara sobre el modelo de prisiones que no podemos estar de acuerdo seguramente

de prisiones y hay un montón de resoluciones en ese sentido o sea yo creo que

que sé que un proceso en el que señor erkoreka tuviera que venir aquí al de tres meses a abordar solo

que todo el mundo compartimos que hay que abordarlo y trabajarlo sobre todo desde una manera preventiva no se va a poder resolver ni solo desde el punto de vista policial ni siquiera en tres meses

no se lo puedo garantizar pero a mí lo que me gustaría es que en un tema que

de acuerdo podamos acordar en alguna otra ocasión alguna iniciativa común para abordar este fenómeno usted tampoco se ha puesto en contacto con el resto de los grupos tampoco hemos tenido un diálogo muy amplio que digamos con los grupos del gobierno es una oportunidad

con las partes positivas y negativas de lo que se está haciendo para seguir haciendo lo mismo por tanto no va a cambiar nada después de la aprobación de esta iniciativa y nosotros nos abstendremos
en la iniciativa de los grupos que apoyan al gobierno eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

yo creo que usted cuando hizo esta iniciativa se precipitó y quizás

en su réplica pero yo creo que en la iniciativa no lo reflejó no lo ha hecho bien

ese giro y podemos seguir hablando en esta y en otras ocasiones como usted ha anunciado sobre

usted planteó crear una unidad específica y dice exactamente para luchar contra las bandas juveniles organizadas y violentas esto no es la prevención

no es una política que deba de darse solamente desde la policía

desde el conjunto de la sociedad es una política transversal es una política que tiene que ir a las causas que pueden motivar el que se den esos comportamientos de violencia que son múltiples y que por lo tanto obedecen a todos los ámbitos obedecen al ámbito económico al ámbito social al ámbito educativo a todos los ámbitos no creo que esta prevención sea razonable encomendársela a una unidad específica

porque no tendría capacidad para hacerlo y además no es esa su función y su misión este es el planteamiento que usted nos ha hecho el de una unidad específica

organizada y bueno como le hemos explicado

ha sido una precipitación porque no viene precedido de un fracaso policial sino que viene precedido de un éxito policial por qué a continuación de lo que ocurre en amorebieta

porque hay un trabajo pero un trabajo de años un trabajo en el que cuando un sindicato de la policía dice que hay cuatro bandas organizadas y veinte

pandillas es que esas bandas que están organizadas esas plantillas la policía las tiene detectadas

y por eso cuando se produce un suceso como el que ha ocurrido se puede actuar rápidamente obviamente actúan a raíz de que hay un delito porque ese es el papel que tiene la policía el actuar

ya que la prevención en algunos casos también como usted sabe es absolutamente imposible usted sabría decirnos cómo se puede prevenir que alguien saque del bolsillo una navaja y se lo clave a otro usted

que una persona por mirarle de una determinada manera

usted sabría cómo prevenir esas actitudes violentas injustificadas absurdas sin ningún tipo de motivación que las vemos muchas veces en las imágenes del metro o en otros sitios sin ir ya a otras violencias que pueden tener

otra causa y que puede tener una animadversión cultural o que pueden tener una confrontación cultural cuando la violencia se dirige hacia personas de

bien pero como usted bien sabe hay muchas veces

que dependen del comportamiento personal individual de ese ciudadano o ciudadana y por lo tanto esa prevención es absolutamente imposible yo

es un proceso que es un suceso que estaba planificado y por lo tanto según su conocimiento se podía prevenir pero yo creo que ha mezclado unas cosas con otras

como consecuencia de que ha traído una iniciativa quizás a golpe de titular de periódico pero no desde una suficientes reflexión gracias

lleva poco tiempo en el partido popular pero ha experimentado yo creo que uno de los procesos de inmersión más rápidos que he conocido porque ya ha hecho suyo

uno de los mantras del partido popular que no es otro que

por generar en la opinión pública más allá de lo que cuantitativa y cualitativamente y de una forma objetiva

por generar un estado de opinión no deja de ser curioso que quienes más se han esforzado por

sus efectivos a día de hoy pues se convierta en el azote de la delincuencia y en el adalid de la seguridad pero bueno veremos hasta dónde les lleva ese proceso

meteórico como les decía aquí se ha hablado también de formación y solamente les voy a poner algunos ejemplos de la formación que recibe la ertzaintza los subertzainas y también los alguaciles

por ejemplo en el plan de carrera ofreciendo en el año dos mil veinte

cursos de tratamiento policial de las personas menores cursos de perfeccionamiento y actualización sobre bandas juveniles organizadas violentas dedicado

en las memorias de la fiscalía que me consta que usted se las ha leído señor gordillo seguramente

de la policía vasca invertir en formación es invertir en

tienen la misión de protegernos en las calles

no se viene trabajando desde hace tiempo hay un camino recorrido hay una apuesta hecha no le vuelvo a recordar lo que se dice en el plan de seguridad que ya se lo hemos recordado en el primero de los turnos

no se puede cambiar las líneas de organización de actuación de cualquier

no se puede no es la mejor de las opciones y desde luego no es nuestra opción

euzko abertzaleak en este momento lo que para finalizar lo que pedimos desde nuestro grupo y animamos

es que continúe la línea de trabajo que está realizando ya que como decía el señor prieto está siendo efectiva eskerrik asko

se estaba demandando esta unidad desde los sindicatos desde fiscalía órganos judiciales sabemos que desde los sindicatos desde un sindicato concreto sí que se ha demandado

judiciales o la fiscalía y lo único que he encontrado que es la fiscalía pide fomentar la coordinación de distintos servicios públicos y privados utilizar sistemas de mediación negociación

movilizar la comunidad y termina diciendo utilizar el sistema de justicia penal es decir la respuesta policial solo cuando resulte

del sistema penal o policial pero es más hay una instrucción de la secretaría de estado de la seguridad que dice etiquetar el problema bajo una sola respuesta

parece estar lejos de aportar respuestas efectivas eta are gehiago

creo que usted nos ha venido aquí a contar porque yo le pedía que nos dé un solo ejemplo de una policía que tenga una unidad de estas características y usted me ha respondido en cierta manera con la historia de la unidad menguante quiero una unidad y si no puede ser una unidad que sea un grupo dentro de una unidad y qué es lo siguiente un especialista dentro de

yo creo que ha diluido tanto la reclamación que usted hacía que pongo en duda precisamente cuál era el foco que usted quería poner y si no es como se ha mencionado

si sería la criminalización de la juventud y generar alarmismo y sensacionalismo al calor de unos hechos concretos

que están enfocando en un sector concreto

el movimiento contra la intolerancia indica que existen doscientos bandas de ultraderecha en el estado español que cuentan

integrantes y no son tan jóvenes y no son tan jóvenes

y genera víctimas concretamente ochenta y uno en los últimos treinta años en todo el estado y genera una percepción de inseguridad y de miedo pero no tanto porque parece que a ustedes no les preocupa tanto

parece que no quieren poner ahí el foco porque precisamente lo quieren poner en otro sitio

sustituzioa si es un planteamiento de cooperación o de sustitución es decir si van ustedes a asumir todas esas competencias que todavía se siguen arrogando la guardia civil y la policía nacional y que ustedes mismos valoran como una dentro del plan general de seguridad dos mil veinte dos mil veinticinco o si van a ir a un esquema de sustitución en el cual les van a achicar todas esas competencias les van a achicar todos esos espacios de intervención

controlando todas las actividades policiales que se practican en este territorio eta hori izango da beste momentu batean eduki beharko dugun gogoeta edo eztabaida